nahi ditugu ante la trágica noticia del asesinato en burkina faso

el parlamento vasco quiere trasladar sus más sinceras condolencias

a quienes como david y roberto trabajan diariamente en la defensa de los derechos humanos

y que se hace aún más necesaria en aquellas zonas que viven en conflicto recordamos también a los las profesionales de los medios de comunicación que son perseguidos

en esta vida hay pocas cosas más ingratas que pronosticar desgracias porque pueden pasar dos cosas

o que aciertes y quedes como un listo si fallas

que siempre estás pensando mal que eres un pesimista que siempre pones problemas

capitán a posteriori y encima tienes que aguantar las consecuencias efectivamente

de la desgracia pronosticada tan desagradable es eso de pronosticar desgracias que la mitología griega cómo no tiene su correspondiente personaje y su correspondiente mito al respecto

de ver el futuro pero tenía la maldición de que nadie le hiciera caso nosotros y nosotras en euskal herria bildu evidentemente ni somos adivinos ni lo pretendemos pero es cierto que en referencia a la evolución de la empresa euskaltel pronosticamos una desgracia la desaparición de euskaltel como empresa vasca

se ha cumplido esta que hoy vamos a debatir hoy aquí es la vigesimoquinta iniciativa que presenta euskal herria bildu al respecto de la empresa euskaltel

ez dute jokatu leialtasunez baizik eta trikimailu eta ziria sartzen saiatzen y no me estoy refiriendo solo a los fondos

internacionales de inversión que en determinados o en varias fases del proceso de desaparición de euskaltel como empresa vasca han intervenido no estoy hablando de que el problema sea la codicia desmedida de estos fondos de inversión porque eso era lo esperable los fondos no voy a decir que no engañen los fondos engañan

porque solo hay una cosa que está clara en los fondos es que tienen una estrategia de ganar el máximo dinero la máxima rentabilidad en el menor número de tiempo posible los fondos no venden

a costa de lo que sea por tanto mienten pero no engañan los fondos son pirañas son pirañas que están genéticamente programadas para devorar a sus presas y sacar el mayor botín posible

acabar devorado por las pirañas lo que no tiene que hacer es meterse en una piscina llena de ellas a no ser que alguno juegue como han jugado algunos aprendices de brujo o peor aún pretendan luego con los huesos o los despojos que dejan los fondos hacerse

con bonus y plusvalías de los fondos no esperábamos nada del gobierno vasco y de kutxabank sí beraien partetik espero genuen koherentzia minimo bat

nos ha llevado la posición del gobierno vasco ante la pérdida de euskaltel league del despropósito mientras en los países normales

para evitar la pérdida de empresas estratégicas la venta a capital externo de empresas estratégicas aquí se celebra como una clasificación

hay declaraciones de algunos relevantes dirigentes políticos de este país que se atreven a decir que sin esta operación euskaltel iba a dar

creo que este tipo de declaraciones retratan aparte la clase política de este país como una clase política más cualificada para hablar del bostj que del bostg esto no va a mandar memes más rápido que también sino de la capacidad de nuestra sociedad de nuestro sistema educativo de nuestra red de ciencia tecnología e innovación

para tener acceso a los servicios telemáticos más avanzados posibles en el momento esto va de vivir mejor de aprender mejor de investigar mejor y de producir mejor porque la revolución tecnológica en buena medida pivota en torno a las telecomunicaciones que serán las que abren la puerta al despliegue de otro tipo de tecnologías

que todavía a algunos le pueden parecer de ciencia ficción pero que a día de hoy se están desarrollando ya y aquí también por parte de empresas nuestras como la inteligencia artificial la realidad virtual realidad aumentada iot robótica

en qué nos beneficia que másmóvil haya absorbido a euskaltel

másmóvil es una empresa low cost fortísimamente endeuda con más de seis mil quinientos millónes de deuda que no es puntera

que no tiene apenas capacidad de servicio a las empresas porque aquí asociamos euskaltel al móvil y al fijo y a la tele en casa pero euskaltel fundamentalmente es una empresa que presta servicio a otras empresas y además másmóvil no está pensando ni en el arraigo como decía en otra intervención anterior ni en los frontones ni en los patrocinios ni en dar atención en euskera másmóvil lo que está pensando es

a ver si va a poder comprar en vez de fusionar que es en lo que estaba hasta hace dos días de la compra de euskaltel es decir másmóvil está pensando en el segundo pelotazo y no va a perder ni una décima de segundo en pensar en el bienestar de euskal herria y si mantiene marcas y enseñas será porque eso desde un punto de vista comercial le va a resultar interesante

quitando esas marcas y haciendo desaparecer por completo a euskaltel lo haría puede ser

en el mundo globalizado es necesario que venga a un gigante y te compre

pues nosotros desde euskal herria bildu desde luego creemos que sí se puede y se está haciendo y hay constatación empírica de empresas vascas de un tamaño medio que son líderes y algunas necesitarán alianzas de hecho euskaltel tenía alianzas

una empresa vasca ni a nivel tecnológico ni de infraestructura va a ser capaz de materializar todos los desarrollos necesarios para llevar adelante su actividad pero puede ser una empresa fuerte que a través de alianza acceda a tecnologías y a otras cuestiones que pueda necesitar

aernnova porque se van llenando sus consejos de administración sus consejos accionariales de capital extranjero y de fondos alguno podría decir que si las empresas vascas son demasiado pequeñas para sobrevivir en el mundo global lo mismo se podría aplicar a este país un país demasiado pequeño

y de independencia nosotros pensamos justamente lo contrario que tanto como las empresas vascas

también los países pequeños y medianos son los que mejor funcionan en el sentido de dar a sus ciudadanos una mayor calidad de vida jaurlaritzaren papera oso tristea izan da

ezkutatzeko másmóvil estaba a la fusión de vodafone hasta primeros de marzo en qué momento euskaltel es incapaz de dar

el gobierno vasco tiene la revelación de que todo lo que venía diciendo hasta entonces de que euskaltel se iba a afianzar en el estado y que iba a ser bueno de que eso ya no vale y que lo que hay que hacer es

en base a qué estudios en base a qué reflexiones qué día de la semana pues fue el día de la semana en que le llamaron y le dijeron que la operación estaba en marcha y entonces toca cambiar improvisar un nuevo argumentario y creo engañar a la sociedad vasca una metáfora de la actitud de un gobierno que vive de rentas y de inercia y que cae en cuanto se acaba la inercia y que compensa sus carencias de dirección de liderazgo y de visión estratégica de país con propaganda guk ez dugu uste

voy a definir en nombre de mi grupo parlamentario la historia de euskaltel con palabras gruesas que atienden a la verdad un expolio a lo público para beneficio de capitalistas y especuladores financieros el mito del oasis vasco con su excepcional estado de bienestar y su arraigada

contrastan con la realidad financiarizada en la que se siente y palpa el neoliberalismo salvaje la opa sobre euskaltel es una buena prueba de ello

supone el último capítulo de una estrecha relación entre las élites locales que se han apresurado a señalar que ven con buenos ojos la opa

internacionales no tiene en nuestra opinión un pase que la consejera de desarrollo económico asegurarse que se ha seguido de cerca esta operación

ya que se trata de un acuerdo entre empresas del país ni han seguido de cerca la operación porque no pintan nada ni es un acuerdo entre dos empresas del país es un acuerdo entre capitalistas y especuladores que no tienen más patria que el poderoso caballero

un último capítulo a todas luces previsible hacía referencia a ello el señor casanova y desde luego nosotros le damos la razón

de este mismo parlamento sobre esta historia privatizadora de una política

que tanto molesta a algunos cuando se lo señalamos neoliberal política neoliberal pura y dura cuando hablamos continuamente de políticas

hablamos de un tipo de políticas concretas no es un insulto y lo cierto es que la realidad actual de euskaltel es el resultado de una política concreta una política claramente neoliberal donde la administración pública actúa al servicio de intereses privados bajo la falsa argumentación de las bondades del llamado libre mercado hace ya unos cuantos años

cuya creación pagamos a escote vascas y vascos con dinero público no es ya propiedad aunque fuera de manera indirecta de todas y de todos hace tiempo que propietarios particulares mayoritariamente inversores capitalistas

de esta empresa si el objetivo de la empresa euskaltel era en origen prestar un servicio público en el campo de las telecomunicaciones lo cierto

tenemos que decir que el objetivo de euskaltel es obtener beneficio para sus propietarios ese y ningún otro lo que ahora está pasando con esta

es un capítulo final de toda esa trayectoria de privatización de recursos públicos de la que el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular han sido partícipes

ha presentado enmienda alguna a la iniciativa del señor casanova qué van a decir que en el último debate que tuvimos en este parlamento sobre esta cuestión

nos aseguraron que el arraigo estaba garantizado con un porcentaje de participación de kutxabank y socios minoritarios muy amigos nuestros nosotros

y con anterioridad que no hay posibilidad alguna de garantizar el famoso arraigo si no hay un control público mantener el centro de decisiones en euskadi no garantizaba nada si el juguete estaba en manos de fondos de inversión privados como ya sostuvimos en el año dos mil diecinueve

solo ha sido posible gracias al papel activo e imprescindible jugado por el gobierno vasco y kutxabank durante años en todo ese proceso privatizador

euskaltel ha pasado de ser una empresa creada con fondos impulso y en parte fines públicos a estar bajo el control de capital especulador internacional

a abrir zanjas con dinero público para instalar una red propia de telecomunicaciones de fibra óptica allá por mil novecientos noventa y cinco presentaba a euskaltel

que afrontaría la digitalización de los organismos autónomos el gobierno vasco entraba como socio mayoritario con un cuarenta por ciento del capital social

controlaban el otro sesenta por ciento veintiseis años después la empresa es controlada en su totalidad por fondos especulativos internacionales cómo se llega de una situación a otra el papel del gobierno vasco y de los partidos partido nacionalista vasco partido socialista

ha sido el que lo ha posibilitado no por errores cometidos nosotros pensamos que no se tratan de errores sino porque esa es la política que se ha practicado y ahora solo queda decir es el mercado amigos

propuso al parlamento vasco la venta de la fibra óptica vasca por el equivalente en acciones a sesenta y ocho millónes de euros la enajenación

en una diputación permanente de este parlamento vasco gracias a los votos de estos tres partidos

por el incumplimiento de un contrato con la compañía orange

a la entrada a euskaltel de grandes capitales internacionales

de la empresa la participación de lakua se vendió por una cifra ligeramente superior a los veinticinco millónes de euros el gobierno entonces nacionalista entregó toda su participación en la empresa por un tercio del valor de las acciones que había adquirido a cambio de la red pública de telecomunicaciones apenas un par de años antes

a los capitalistas el grupo financiero icv se hacía con el cuarenta y uno por ciento de la teleco vasca por apenas doscientos millónes de euros solo tres años después

un negocio redondo desde entonces y hasta la fecha el reparto de dividendos millónarios a los socios capitalistas ha sido la tónica habitual año tras año

de euros mientras tanto euskaltel ha venido realizando durante años duros procesos de ajuste en el empleo y en las condiciones laborales de su plantilla

que han adoptado en ocasiones la forma de subcontrataciones a través de las cuales empleadas y empleados pasaban a otras empresas dejando de pertenecer a la propia plantilla de euskaltel en estos momentos es un auténtico insulto el contraste

con el reparto de veintisiete millónes de euros en bonus entre cuarenta directivos de la empresa por la operación de venta josé miguel garcía se embolsará siete millónes y medio de euros

de euros las subidas salariales que plantean los representantes de los trabajadores rondarían los doscientos sesenta mil euros contrasta esta cifra

en bonus que algunos se van a repartir la dirección de euskaltel ha actuado guiada con objetivos exclusivos de rentabilidad para los accionistas y el cobro de bonus de directivos año dos mil veintiuno veinticinco millónes de euros repartidos entre sus accionistas

año dos mil diecinueve otros cincuenta y cinco millónes de euros repartidos entre sus accionistas año dos mil dieciocho cuarenta y nueve millónes de euros repartidos entre sus accionistas

y todo esto se ha hecho estando supuestamente el centro de decisión en euskadi pero en manos de intereses privados que es lo realmente importante

es lo que hemos venido defendiendo en todo momento porque lo que nació con dinero público no debería acabar siendo un negocio privado para algunos pero esa es en definitiva

impulsadas y practicadas en euskadi por su gobierno al respecto la política productiva y la valorización del trabajo han perdido

para extraer cuantiosos beneficios especulando con lo que fueran en su día activos públicos de la mano de sus aliados políticos por eso nosotros presentamos una enmienda a la totalidad y hemos transaccionado con el grupo proponente porque estábamos

que era muy importante que este parlamento hoy después de esa operación se manifestase al respecto en estos términos besterik ez

buenos días señorías hace una semana trasladábamos desde esta tribuna

y la desindustrialización de la margen izquierda decenas de planes de empleo y de reindustrialización y resultados menguantes cuando no inexistentes

cinco diputados de una región española que cuenta con un sistema de financiación muy particular apoyaron la constitución del primer gobierno del partido popular para que este

euskaltel pero lo que se gana en los despachos en despachos

se pierde en los mercados el modelo de bienestar vasco no es capaz pese a su capacidad de financiación de crear y o mantener

valor añadido y que este valor añadido se quede en nuestra tierra en este caso las inversiones se han hecho desde cero aquí en el país vasco la compañía ha cogido tamaño

otros fondos y las han comprado sin duda el gobierno vasco podía haber salvado esta operación otra cuestión es que haya querido o no hacerlo

la pena mantener por su arraigo con toda seguridad el gobierno vasco podría haber utilizado el fondo que tiene para participar en empresas como ya hizo en su momento con caf o con kaiku y kutxabank

pese a tener la obligación de recortar su presencia en euskaltel por mandato del banco central europeo ha hecho caso omiso al objetivo estratégico de mantener el arraigo de la empresa en nuestro territorio renunciando a su particular conciencia

los gobiernos autonómicos se han convertido en marionetas de las multinacionales globalistas

recompensados generosamente con nuestro trabajo nuestro patrimonio y nuestro talento a precio de saldo el resultado de esta operación es evidente una cantidad ingente de dinero público dilapidado pérdida de talento y por supuesto desarraigo y por último unos incentivos inaceptables josé miguel garcía se llevará el veintiocho por ciento del total mientras que el presidente del consejo de administración xabier iturbe otaegi se quedará con un cuatro por ciento

como la opa lanzada por másmóvil es sobre el cien por ciento de las acciones de euskaltel y el precio de la oferta es de once coma quince euros por título

es de mil novecientos ochenta y seis millónes en el plan de incentivos se fijaba como medida la capitalización bursátil entre el cinco de junio de dos mil diecinueve y finales del dos mil veintidós

la revalorización calculada ahora por distintos medios es de seiscientos setenta millónes como ha dicho el señor hernández y yo les refresco

será gratificada con unos veintiséis coma ocho millónes de euros

millónes y xabier iturbe más de un millón de euros

estamos hoy en una sesión casi de epitafio de euskaltel

cuál ha sido la trayectoria de esta empresa que es verdad que está llena de cambios de opinión está llena de incluso de falsedades y también de giros inesperados me gustaría comenzar

en la interpelación que origina esta moción es decir hace muy poco tiempo el lehendakari dijo la pasada semana

euskaltel nació en mil novecientos noventa y tres en mil novecientos noventa y cinco perdón impulsada por el gobierno vasco con un cuarenta por ciento de participación en su capital por lo tanto dijo ni

esta afirmación como ustedes saben contiene dos imprecisiones perfectamente calculadas la primera de ellas creo que todos conocemos la historia es obvia la creación en mil novecientos noventa y dos de euskalnet según el decreto trescientos ochenta y cinco barra mil novecientos noventa y dos de quince de diciembre

de la comunidad autónoma del país vasco tampoco se hace referencia a las sucesivas ampliaciones de capital realizadas por euskalnet a cargo de los contribuyentes vascos

millónes de pesetas lo que equivaldría a día de hoy a más de noventa y tres

y se repitieron estas ampliaciones en el año noventa y cuatro noventa y cinco y noventa y seis euskalnet firmó un contrato con euskaltel por el acuerdo de fecha veintisiete

el consejo de gobierno de euskalnet cedía en arrendamiento a euskaltel como ya se ha dicho las redes de transporte y conmutación de señales de voz y datos

recordemos que euskalnet estaba participada al cien por ciento por la administración pública vasca en dos mil doce finalmente se acabó vendiendo la red de fibra euskaltel por sesenta y ocho millónes de euros

tuvo mucho que ver en la venta de los activos de euskalnet y tuvo mucho que ver en la venta de su participación en euskaltel en el noventa y cinco sí es verdad que era del cuarenta y cinco por ciento en esa fecha

restante de euskaltel era de bbk de la kutxa y de caja vital y los activos con los que contaba euskalnet euskaltel perdón para realizar su actividad provenían de euskalnet

durante los años noventa y por ello sí que esperamos que explique si toda la inversión pública para alcanzar esa supuesta

y les adelanto la respuesta a la luz de los hechos relatados y por todo el mundo conocidos la gestión del gobierno vasco en todo esto ha sido una verdadera chapuza

desde dos mil doce es el mercado el que decide el futuro de euskaltel y no podemos en dos mil veintiuno

que tiene dueños y que han pagado por ello como si fuese una empresa pública

no tiene ningún efecto práctico no solo porque creemos que no va a salir sino también porque solo tiene el objetivo de castigar de desgastar al gobierno

de este tipo que se presenta aquí la última la vimos efectivamente la semana pasada

la situación sanitaria y económica tiene a muchos de nuestros conciudadanos pasándolo mal

y nuestro dinero o su dinero a ayudarles de forma más efectiva

pero es verdad también lo que se ha dicho de que revisando la documentación se queda uno impresionado de la cantidad de horas y la cantidad de iniciativas que se han dedicado en este parlamento a hablar sobre esta empresa el señor casanova ha dicho que había veinticinco es decir yo creo que he

así que centrémonos en la situación actual de la empresa como todos sabemos el mes pasado se hizo público que le compañía másmóvil había lanzado una opa que la posición de los accionistas más significativos era favorable a la adquisición

que euskaltel ha sido comprada por una empresa más grande del sector de las telecomunicaciones

objetivamente se trata de una operación entre dos empresas privadas que no debería formar parte del debate público y sobre la que nosotros nos abstenemos de opinar completamente sin embargo siguiendo la situación actual la historia de la empresa

se creó con la vocación y hay que decirlo claramente de constituir una pieza fundamental en el proceso de construcción nacional

y que explica el porqué seguimos aquí

es decir desde que nació euskaltel fue un proyecto al servicio de la mayor gloria del nacionalismo se trataba de alcanzar una supuesta y quimérica soberanía vasca en el terreno de las telecomunicaciones como también se pretende en el terreno de la energía o de la sanidad por poner algunos ejemplos que se premiara con su presidencia

lo muestra bien a las claras ellos y otros se encargaron siempre de que la empresa estuviese

mejor que no hablemos por eso ahora hablamos tanto de desarraigo porque en dos mil doce se perdió el control político definitivamente

y ahora bildu llega nueve años más tarde a reclamar no sé qué exactamente porque como les he dicho al inicio de mi intervención esa iniciativa no tiene ningún tipo de repercusiones sobre el proceso abierto se están especializando en el parecer que hacen en vez de en hacer señor casanova

de los presupuestos su silencio en forma de enmiendas fue atronador

de uno y de otro grupo no se pueden poner puertas al campo en seguida se vio la necesidad de incorporar socios tecnológicos y un poco más tarde la necesidad de crecer para poder competir en un mercado un mercado que algunos llaman neoliberal

es el mercado el mismo mercado que hace que ellos y nosotros compremos las cosas

en medio se gastaron muchos cientos de millónes de euros de dinero público en una red de fibra óptica de cerca de quinientos kilómetros pagados por todos los vascos es verdad y que posteriormente fue vendida a precio de ganga sin un proceso de oferta pública

pero el fracaso de euskaltel como proyecto público puesto al servicio de los intereses políticos del pnv

al gobierno vasco y al pnv que deberían dar a la ciudadanía una explicación y una reparación proporcionada así como explicar con detalle las repercusiones económicas que este proceso de venta va a tener sobre euskadi porque las va a tener

es de todos los ciudadanos obviamente vamos a votar no a esta moción sin sentido a la que no hemos considerado que mereciera la pena

con la esperanza de que todos aprendamos la lección y de que una historia de este tipo no vuelva a repetirse de cara al futuro solo deseamos que a euskaltel le vaya bien

que le proporcionen la solidez y la calidad de gestión y la estabilidad que la empresa

que sean capaces de poner la empresa al servicio no de unos pocos sino de todos sus clientes y que sean capaces de generar mucho empleo y mucha riqueza para euskadi muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta buenos días lehendakari vicelehendakari buenos días consejera miren el título de la moción
es en relación con la posición del gobierno ante la venta de euskaltel la interpelación

ante la desaparición de euskaltel como empresa vasca y bildu resuelve este enigma pretendiendo que el parlamento exprese su malestar

dos consideraciones una manifestación de interés y proponiendo la ratificación de un acuerdo

hace tres años todo ello sin instar al gobierno a adoptar ningún posicionamiento o realizar acción alguna y es curioso que solo se proponga ratificar uno de todos los acuerdos que hemos adoptado en relación directa o indirecta con este asunto

interpelación que había cuatro hitos en el devenir de euskaltel

señor casanova de muchos de los debates que de forma directa e indirecta hemos tenido en este parlamento con decisiones democráticamente adoptadas por la mayoría de este parlamento cuatro hitos en los que el gobierno vasco y el parlamento ha actuado siempre conforme a derecho a las directivas europeas en base a la coyuntura económica con responsabilidad y bajo el principio de realismo teniendo claros tanto el gobierno como los grupos parlamentarios que lo sustentamos tanto nuestros compromisos como los objetivos con el desarrollo industrial de euskadi y con el empleo primer hito

autorización al parlamento vasco para la transmisión a euskaltel de la red de telecomunicaciones e infraestructura excedentaria

que eran propiedad de la administración el parlamento vasco autoriza la transmisión de la red e infraestructura excedentaria así como la venta de las acciones propiedad

contiene un informe con la memoria explicativa de la propuesta de autorización

antecedentes descripción de la operación propuesta posibilidad de enajenación subsidiaria de la red de infraestructuras de telecomunicaciones propiedad de la comunidad autónoma el objeto

e infraestructuras y la necesaria autorización previa del parlamento así como termina con una serie de conclusiones aquella operación en dos fases

a nadie aquello fue una venta que revalorizó las acciones de euskaltel y también el patrimonio público del gobierno vasco que permitió la entrada de inversores en la empresa y saldar además una deuda por sanción que fue avalada con una autorización de este parlamento

número de votos segundo hito con motivo de la salida a bolsa de euskaltel en octubre de dos mil quince en el parlamento la mayoría parlamentaria de esta cámara adopta los siguientes acuerdos

oportunas las autorizaciones concedidas al gobierno vasco el trece de agosto de dos mil doce tanto para la transmisión a euskaltel de la red de telecomunicaciones e infraestructura excedentaria

propiedad de la administración de la comunidad autónoma de euskadi otro acuerdo el parlamento vasco considera oportuna la salida a bolsa de la empresa euskaltel

facilitará su acceso a más fuentes de financiación y su crecimiento y desarrollo futuro tercer acuerdo

de la mejora de la competitividad de las empresas pero también con la construcción de un modelo de sociedad más igualitaria y justa en términos sociales y económicos otro acuerdo el parlamento vasco considera que la empresa euskaltel y sus equipos directivos tienen un compromiso con la sociedad vasca por el apoyo concedida por esta el nacimiento y desarrollo

se mantenga la vinculación de la compañía con euskadi y se traduzca en creación de empleo y apuesta por el desarrollo e innovación otro acuerdo con respecto a esa salida a bolsa

ha de establecer un clima y unas condiciones laborales de calidad en su organización otro acuerdo de la salida de bolsa el parlamento vasco insta al gobierno vasco a continuar impulsando la creación de nuevas empresas especialmente en sectores estratégicos y emergentes con la participación y asunción de riesgo empresarial tanto por parte del sector público como el sector privado

en la que se planteaba que el arraigo de la empresa a euskadi necesitaba un setenta y cinco por ciento del accionariado para cambiar las condiciones

se hace además un reproche institucional para que los bonus conseguidos entonces cuarenta y cuatro millónes de euros se inviertan en la empresa cosa que se consigue otro hito tercer hito el seis de junio de dos mil diecinueve volvemos a tener un debate en este parlamento sobre las medidas a tomar

y entonces el parlamento vasco aprueba otra enmienda hace un acuerdo que dice el parlamento

en aras de garantizar el compromiso con el empleo la inversión la investigación el avance tecnológico y el desarrollo de euskadi

para lograr optimizar el atractivo de euskadi como territorio óptimo para el asentamiento de arraigo de empresas tractoras el parlamento además insta al gobierno

que teniendo como objetivo un modelo productivo sólido saludable y sostenible del país vasco

significativa y sostenible en las empresas estratégicas para garantizar su vinculación al territorio y asegurar la permanencia de su capacidad de decisión en euskadi

su devenir y que hoy tiene un compromiso ya claro y específico y está en marcha en noviembre volvemos a debatir en este caso con una moción sobre las medidas a adoptar por el gobierno para que la red de telecomunicación

el parlamento insta al gobierno a analizar con profundidad la compra de participaciones de la empresa euskaltel al objeto de garantizar el arraigo de la empresa e intentar evitar en lo posible la venta de la red de telecomunicaciones de euskadi cuarto hito

interpelación la opa amistosa de másmóvil a euskaltel

lo que a nuestro modo de ver importa mucho y lo que más importa son garantías que haya garantías para el empleo de euskaltel no habrá la supervivencia de la empresa está concedida y de la marca

y por tanto también hay un compromiso de inversiones entre otros ámbitos en la red

de todas las explicaciones oídas hasta ahora de las informaciones que hemos leído y de las opiniones dadas los socialistas vascos hacemos varias consideraciones primero que euskaltel no desaparece euskaltel será una empresa con marca propia sede fiscal y social en euskadi el empleo la actividad las inversiones los servicios y los clientes

de la empresa másmóvil hay un compromiso claro también del gobierno de trabajar para aprovechar la nueva situación de euskaltel ofreciendo ayuda para la continuación de las condiciones más allá del plazo de esos cinco años otro tema la apuesta por la transformación tecnológica y digital del gobierno por el despliegue

por la inteligencia artificial por el desarrollo del sector de las telecomunicaciones

son compromisos claros y específicos del programa de gobierno y están alineados con las estrategias y políticas tanto las que realiza el gobierno del estado como en europa el compromiso con la digitalización se ha recogido en el plan de ciencia tecnología e innovación dos mil treinta disponemos de la estrategia para la transformación digital de euskadi dos mil veinticinco

y los socialistas vascos nos posicionamos en la generación de un ecosistema científico tecnológico y empresarial

y que desde la perspectiva pública favorezca el arraigo empresarial desde la colaboración con el sector privado para ello hay instrumentos últimamente la sociedad

que serán sin duda herramientas que contribuirán al desarrollo del tejido empresarial tractor y estratégico de euskadi y a su arraigo el sector de las telecomunicaciones y un sector que tiende a la concentración

único para competir a nivel mundial china tiene tres operadores estados unidos tres compañías europa va por los ochenta grandes operadores por tanto un mercado europeo que tiene que reforzarse

y desde el principio del realismo esta operación de culminarse supone un reto pero también una oportunidad es indudable que si estamos tratando

músculo en capacidades tecnológicas y en oportunidades de digitalización para euskadi es una operación que incluso se ha considerado positiva por parte de confebask

al que se ha llegado con un alto nivel de consenso entre los accionistas y porque sitúa euskaltel en otro nivel en el campo de las telecomunicaciones efectivamente los retos son importantes la digitalización la inversión y la capacidad técnica se alinean de impulso al sector todos esperamos que esto acabe siendo una buena noticia para el enraizamiento de ambas empresas para el país y para la sociedad en su conjunto gracias

y señor hernández han querido visualizar aquí que nos han robado la cartera y además lo han hecho con la connivencia del gobierno vasco es un poquitín el mensaje que han venido a trasladar hoy aquí

más alejado de la realidad euskaltel es una empresa que se ha duplicado duplicado duplicado duplicado duplicado y duplicado hasta en seis ocasiones su tamaño en los últimos veinticinco años

al contribuyente vasco de forma directa o indirecta de seiscientos millónes de euros y ha supuesto unos beneficios que no se pueden cuantificar a todos los consumidores vascos porque han roto

telefónica y han supuesto por ejemplo que la red de fibra se haya desarrollado aquí mucho más rápido que en otros lugares por tanto estamos ante un enorme éxito económico y éxito también político porque quiero recordar también lo ha hecho el señor gil que esto nació en la investidura en una

y aznar porque la única barrera de entrada al mercado no era una barrera

regulatoria política y por tanto esa barrera se superó lo superamos como país y podemos hoy hablar de un éxito rotundo porque en el caso de euskaltel hemos privatizado los riesgos

por ciento de la kutxa pero la concepción desde la incubadora

desde el comienzo era la de dar acceso a inversores privados precisamente

para privatizar los riesgos al contrario de cómo se han hecho en otros lugares

estoy hablando de concesiones de autopistas de banca etcétera euskaltel gobernuak jarri zuen

vamos a jugar en nuestro país a ser cabeza de ratón pues en el sector de las telecos es imposible

hoy hemos conocido en ese sector donde la lucha de precios es brutal y donde la gente tiene costumbre de cambiar de compañía de teléfonos cada dos o tres años

y eso con todas las inversiones y con un montón de personas interesadas en invertir en ella es decir que es una empresa con un grandísimo futuro si no la gente no invierte los casi dos mil millónes de euros que van a invertir pero hoy hemos sabido dos millónes de euros en el primer trimestre eso habla de que es un sector donde ahí sí que hay pirañas

los mejores dientes para morder al resto por tanto qué modelo de desarrollo tecnológico queremos para nuestras empresas y para nuestro país y yo acudo atónito señor casanova

donde por ejemplo su partido y también el partido de elkarrekin podemos ha aprobado una moción

y que es un peligro para las libertades públicas porque los gobiernos nos van a controlar

por tanto o sea qué defienden ustedes la posición sí sí piden una moratoria

donde si pierdes el paso pierdes todo el tren o estamos entre los primeros o estaremos entre los últimos y perderemos las oportunidades que tienen los que llegan primero que en este caso son china y los estados unidos ze bostga ez da bakarrik

beste toki batzuetan egiten duzuenarekin tema bonus el bonus de los directivos en la salida de la bolsa no nos gustaron nada no creo que sea ningún secreto y se puede decir así no nos gustó nada yo entonces era todavía más chaval que ahora pero bueno los que estarían entonces no les gustó nada y creo que intentaron boicotearlo hablo de lo que leo en prensa eh ahora bien

hay una cuestión casi prepolítica no que es que al empresario no le puedes retribuir igual

porque el gestor gestiona el gestor asciende en la empresa y el empresario arriesga y por tanto son dos lógicas diferentes y el hecho de que

durante unos pocos años una empresa pues es un desequilibrio claro del sistema

regúlenlo tienen ustedes competencias señor hernández

desde otra realidad están ustedes en el gobierno tienen ustedes muchos congresistas en el congreso regúlenlo porque son desequilibrios que duelen

no sé un messi por ejemplo ha ganado casi dos mil euros bueno esos son desequilibrios que a uno le indignan un poco sobre todo si previamente

las empresas vienen de despidos o de ajustes no amaitzen dot hausnarketa batekin nik uste dot oso humanoa dela es muy humano sentir

de querer dominar tu realidad y

zientzia ekonomikoak argi dio con lo cual

aprovechando todas las oportunidades y moviéndonos rápido cuando haya que hacerlo y este gobierno siempre ha sido ejemplo de ello también en el éxito que ha supuesto euskaltel euskaltel seguirá siendo una compañía vasca no solamente dentro de dos años

porque les vamos a ofrecer vamos a ofrecerle a la empresa un contexto de prosperidad

un nivel aceptable de beneficios de consumidores con poder adquisitivo y es en eso en lo que tenemos que trabajar ahora

tenga dinero en el bolsillo para gastar eskerrik asko eskerrik asko

se ha cumplido en euskaltel el dogma de la política de la derecha ultraliberal y por tanto el partido popular está contento hoy se privatiza lo público

el pp con telefónica y se debilita euskal herria como país por tanto a usted

le convendría ahora yo creo que el resto entonces a partir de esa constatación

así ha cubierto un poco el expediente de ahí constato dos cosas lehenengoz eta behin

con respecto al pnv yo mire no sé me imagino conocer conocemos todos el libro mil novecientos ochenta y cuatro george orwell me imagino que incluso la mayoría lo habrá leído un libro que

que narra una sociedad totalitaria y hay un episodio que a mí se me bueno prácticamente todo el libro pero este se me quedó muy gravado y es que están en un acto y el orador del partido está hablando y están en guerra contra un país

hemos cambiado de enemigo ahora ya no estamos en guerra y se pone a decir sabotaje las pancartas están mal ese no es el enemigo

ustedes hasta marzo hasta marzo estaban diciendo que el proceso de expansión en el estado era una maravilla y que los compromisos de zegona nos venían de fábula y que ese era el camino

que másmóvil quería compra fusionarse

no se han puesto de acuerdo entonces másmóvil que tenía la pasta ya activada dice pues ahora compro euskaltel

másmóvil va a comprar euskaltel y entonces entonces ahora hay que jugar en la champions

de operadores ahora loas al oligopolio lo pequeño no puede de un día para otro les pasan una nota diciendo que ha cambiado el guion de la empresa

no hay una visión propia del gobierno vasco que sepa diseñar

telecomunicaciones y el papel de empresas clave como euskaltel

la crítica de euskal herria bildu sino del mundo empresarial incluyendo el mundo empresarial

con moción entre otras cosas por los directivos que echaron en su momento pero también hay gente de otras empresas que tiene otra visión de país que no coincide con su

porque se pueden llegar a fusiones incluso y se puede como usted dice crecer una empresa e ir disminuyendo la participación pero cuanto más grande es una empresa más significativa es una participación pequeña y usted con el dos por ciento de iberdrola es capitán general

se puede seguir apostando por estar en esas empresas como apuestan francia y alemania que son los ejemplos que aquí les traigo

con nuestros modelos dijo el otro día en la junta de seguridad yo les hablo de francia y de alemania

veta la venta de empresas estratégicas que francia y alemania tienen dinero en empresas de automoción

sin que el gobierno francés diga lo que hay que hacer o sea que no estamos hablando aquí como decía la señora tapia de comunismo por mantenerse en empresas que son privadas pero que tienen una participación pública orientada a poder incidir en ellas y a poder

implementar además de la lógica empresarial también un cierto sentido de respeto

a unas prácticas sindicales y laborales porque no quiero terminar se me acaba el tiempo sin recordar a esos trabajadores usted decía se han privatizado los riesgos y se han publificado los beneficios se han publificado los beneficios pero quién se ha llevado aquí quién se lo ha llevado crudo si lo de los bonus los setenta y cinco millónes de los fondos que entraron a salvar euskaltel sellaron seiscientos millónes seiscientos más de cien y kutxabank probablemente alrededor de ochocientos

dónde están los beneficios públicos y el gobierno vasco vendió por sesenta y ocho euros lo que ahora

bien yo voy a empezar retomando el tema donde lo ha dejado el señor casanova

no sé si se puede definir daño colateral en todo este proceso privatizador que en nuestra opinión tiene una repercusión absolutamente negativa

público como en lo que de valor añadido para el desarrollo económico del país puede tener que es lo que han sufrido y vienen sufriendo las y los trabajadores

es absolutamente bochornoso ese contraste entre una cifra

suponer la subida la adecuación de los salarios congelados desde dos mil diecinueve con ese reparto de dividendos

entre los accionistas y a ver si ahora el problema de un proceso de privatización de muchos años

del que forma parte mi coalición hace un año no ha regulado para poner tope a determinadas políticas que partidos como el suyo pues han fomentado y de manera muy evidente en este asunto de euskaltel por eso nos parece que desde luego no son juegos florales señor gil vegas es verdad que es una declaración política lo que aprobaría este parlamento

moción pero poco más se puede hacer primero con la correlación de fuerzas y con el histórico que ha habido porque el partido popular ha sido absolutamente responsable también en todo este proceso desde cómo se creó euskaltel a cómo se privatizó euskaltel

prácticos resultados prácticos lo que ha hecho el partido popular que es cómplice de todo este asunto y nos dice además que esto supuso un proceso de construcción nacional

socio necesario de ese proceso de construcción nacional o nacionalista que usted ha señalado no es una cuestión de pelea o de debate entre nacionalistas es un debate entre unas políticas la defensa de lo común

en la defensa de lo privado porque esta última ope

a que es un pacto entre dos empresas del país también lo ha hecho el señor

es un pacto entre los propietarios de esas empresas que son capitalistas financieros que son unos apátridas que no tienen ninguna

y el partido nacionalista vasco nos dice que no podemos desde lo público intervenir en compañías estratégicas que no podemos tener

estratégicas que en el mundo de las telecomunicaciones es imposible que eso impediría el desarrollo necesario de ese tipo de compañías el crecimiento

no ha respondido ni al interés social ni al interés del servicio que debía dar euskaltel y que debe dar euskaltel ha respondido a otras necesidades

han hecho mucho dinero no es cierto tampoco que se hayan privatizado los riesgos y se hayan publificado las

echen cuentas no voy a repetir algunos datos que ha dado el señor casanova

quién ha ganado y quién ha perdido ustedes para defender esto se quedan con algunos casos de empresas concretas pero no reconocen que hay empresas potentes en el mundo de las telecomunicaciones que son públicas

en el mundo hay ejemplos yo voy a poner uno solo el del caso de antel

y respecto al tamaño de la inversión necesaria que ustedes sostienen o usted ha sostenido que no hubiera sido de alguna manera posible

eso nos posibilita no ser cabeza de ratón sino otra cosa es verdad que seis años después gracias también a esas políticas de menos de mil millónes de euros en cambio los fondos públicos

millónes de euros por eso nosotros una vez más hoy en nuestra enmienda

hablamos de banca pública y hablamos de las herramientas necesarias para que desde lo público realizar ese tipo de acciones para mantener el control de empresas que son estratégicas y que deben tener otros fines que no son solo los del lucro privado

financieros eso es posible hay herramientas para tener esas políticas

jugar en primera división en este mundo del capitalismo globalizado otra cuestión es que se quiera defender otro tipo de políticas

casanova lamento desengañarle no no estamos contentos con esta situación no nos gusta en absoluto a ver si va a resultar que

desde el principio ya sé que son muchos años pero yo también tengo muchos años se veía venir esto era evidente

en fin a nosotros no nos parece que este sea un tema

hoy es una operación entre dos empresas privadas

nos guste o no nos guste esta es la actuación realista y bueno habrá hoy

de las que no vamos a hablar hablamos de esta por la historia por el origen por lo que ha pasado antes

pero reconocerán conmigo que revisar la historia solo tiene sentido para aprender de ella y no estoy seguro bueno sí estoy seguro de que en su moción no hay ninguna lección para aprender y sí que creo que deberíamos sacarla sí que creo que de una historia de tantos años de tanto dinero de tantos agentes involucrados tanta incidencia sobre la sociedad vasca deberíamos sacar alguna

el bonus de los directivos a mí tampoco me gusta a mí no me ha gustado

en ciertos ambientes empresariales pero no me gusta no me gusta pero es verdad también que es legal y es verdad también que no hay nada que lo impida y hay tantas cosas en el mundo que no me gustan con las que me tengo que callar y aguantar en fin dicho eso

hoy vemos en la prensa la noticia de que como ya se ha recordado euskaltel entra en pérdidas

menos mal que se ha vendido porque si no nos tocaría

en fin es cierto que estamos hablando de un mercado en el que no es posible competir con tamaños

esto no ocurre para todos los mercados ni para otras realidades

en el que efectivamente solo hay un camino si entras solo hay un camino que es o crecer o morir por qué

porque se ha globalizado completamente y esto nos guste o no nos guste nos merezca un juicio u otro esta es la realidad que debemos asumir y es verdad que euskaltel en un mercado de ese tipo

no había más alternativa que ir al mercado de capitales y por lo tanto claro hay fondos de inversión

cuando vas a crecer en una empresa los fondos de capital te ofrecen dinero

ese es el mercado financiero habitual pero es verdad que es imposible crecer

yo sigo pensando que euskaltel es una riqueza para euskadi y espero que lo siga siendo como lo son otras muchas empresas privadas que operan en nuestro país y que están

como también lo son empresas que no son de aquí y que también dan servicio a nuestros ciudadanos exactamente igual es una riqueza y lo que espero es que en vez de criticar lo que ha pasado o

o hacemos algo mejor todavía que es nos centramos en ver cómo generamos las condiciones para que se generen muchas más empresas

que luego efectivamente se venderán no se venderán siempre y cuando no perdamos dinero en lo público lo que necesitamos efectivamente

gracias presidenta yo repito algo señor casanova

y que además le molesta especialmente y es que repitamos cuáles han sido los acuerdos adoptados por esta cámara

rechace esos acuerdos que se han ido adoptando y a mí eso me molesta especialmente también que usted no reconozca esos acuerdos y por eso se los vuelvo a hacer valer porque creo que

su planteamiento sin tener en cuenta cuáles han sido los acuerdos democráticos adoptados por este parlamento porque el gobierno no actúa porque sí porque los socialistas vascos

no actuamos porque nos dé una ventolera actuamos porque además promovemos una serie de acuerdos que luego en unas ocasiones se digamos aprueban y en otras

por lo tanto yo lo que le sugiero es que respete usted los pronunciamientos de este parlamento yo no sé si cuando se toman esas decisiones supone que somos traidores a una causa que usted ha inventado y que usted ha considerado que hoy nos ha llamado traidores y se ha quedado tan ancho

hacer algo cuando se adoptan las decisiones y se promueven las decisiones adoptadas y acordadas por este parlamento en la iniciativa de hoy señor casanova no había

para el gobierno vasco ni uno solo y en su propuesta de moción no había ni una sola alternativa ni un solo modelo alternativo todo ha sido explicar cuál ha sido su frustración echar la culpa a los demás

el modelo a realizar y pretender la soberanía vasca en el sector de las telecomunicaciones a día de hoy en el año dos mil veintiuno pues permítame que le diga yo creo que es una quimera pero si es que además su objetivo

que el parlamento se retracte de decisiones institucionales adoptadas

yo la quimera la puedo tragar pero el despropósito ya me cuesta más y creo que usted lo entenderá estamos efectivamente en una economía global

ni puede ni debe jugar al monopoly con el dinero de la ciudadanía vasca no puede permitírselo mire la legislatura pasada

que hablaba de cuánto costaría esa participación hablaba se hablaba de ochocientos millónes de euros ahora sabemos que másmóvil pretende una compra del cien por ciento de euskaltel

de euros y contábamos la legislatura pasada

que hablaba de una posibilidad de doscientos cincuenta millónes de euros un fondo público privado hoy estamos ante un fondo de ciento sesenta millónes con posibilidad de ampliarse a lo largo de la legislatura en trescientos pero quá vamos a comprar pero

de qué vamos a participar y yo creo que eso requiere de un principio de realismo y es el que le falta señor casanova y podrá traer trescientos iniciativas más pero seguiremos estando en un debate bastante surrealista porque no querer reconocer la realidad es un verdadero problema y para eso no hace falta el trazo grueso e inculpar y ofender e insultar al resto de grupos parlamentarios

miren nosotros creemos que la administración lo que tiene que hacer ahora de llevarse a efecto toda esta operación es ser vigilante vigilante de que las condiciones que se pactan sean realmente llevadas a cabo que esto no sea que en un par de meses nos olvidamos

creo que no y creo que además el gobierno lo que ha pretendido es trabajar con la empresa de manera que podamos tener más futuro de euskaltel en euskadi en tiempos de incertidumbre como los que vivimos podemos entender como normal

en el sector de las telecomunicaciones aunque esa opa sea realmente amistosa pero si alguna certeza tenemos desde luego los socialistas vascos

tecnológica en la que los gobiernos tienen un importante reto y tienen además compromisos y responsabilidades para el futuro de europa de españa y de euskadi

menos añoranzas soberanistas más altura de miras prudencia responsabilidad y visión de futuro porque nadie nadie

ha puesto en venta euskal herria al menos así lo sentimos los socialistas vascos señor casanova eskerrik asko corcuera andrea

eskerrik asko euskaltel tiene la sede aquí y va a seguir teniendo la sede aquí dentro de

yo no me fío de la lógica de mercado yo tampoco pero sí me fío de las preferencias de los consumidores vascos porque el día que euskaltel se llame dublíntel parístel o madridtel le van a dar sopas con honda le van a dar sopas con honda y eso es la principal fortaleza y esa es la principal justificación del arraigo que va a tener euskaltel no dentro de cinco años sino dentro del siete y dentro de diez porque si pierden eso pierden la clientela señor casanova sí novecientos ochenta y cuatro es posiblemente una de mis novelas favoritas

principal llamamiento de atención

a hacer nuestras propias reflexiones es una pena que no le haya dado tiempo a usted hablar del bostg y a aclararnos sus contradicciones en torno al bostg lo cual me lleva a mí a pensar

porque no quiere usted posicionarse sobre el tema que bildu no tiene

sobre los que no tienen aparentemente posición o sobre los que la posición que ustedes toman

a algunos de ustedes pues porque no tienen un modelo concreto tienen posicionamientos sobre casos concretos por ejemplo el de hoy euskaltel

se solidificó como una estalactita hace ciento setenta años y cada cien años crece un centímetro entonces su modelo de todo público todo público los políticos gestionamos mal las empresas privadas porque el dinero que se juega en el partido no es nuestro

con esto no quiero decir que la participación pública en empresa privada sea mala todo lo contrario antes de ayer la consejera tapia la señora tapia anunció que están por ejemplo que estarían interesados en comprar una participación en itp aéreo por ejemplo hemos hablado de ampliar el fondo finkatuz también el estado tiene

por tanto no décimos que la participación pública en lo privado esté mal pero no puede ser la norma bebe ser la excepción porque si publificamos si nacionalizamos

todos los sectores estratégicos que para ustedes son casi todos pues es que no hay presupuesto público que soporte eso salvo en los países comunistas donde el tamaño

del sector productivo es siempre más pequeño y mucho peor valorado bueno no me da tiempo de hablar de francia y

participaciones privadas en todas salvo en dos tiene una participación menor del veinte por ciento acaba de subir del veinte por ciento klm air france que es su compañía aeronáutica de bandera

pero bueno hay otros casos donde sí hay una participación cien por ciento público correos es pública en fin hay muchas empresas no puede ser esa la norma esa debe ser la excepción entonces

esta iniciativa que presentamos hoy los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos pretende ser altavoz de los nicaragüenses que sufren

y también un acto más de solidaridad como el realizado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho en esta cámara a raíz de los graves sucesos de violencia y represión de ese mismo año en el mes de abril queremos hacer de altavoz porque así nos lo han pedido

que hoy nos acompañan algunos de ellos compañeros y compañeras que están sufriendo esta situación desplazados del país en el que quisieran vivir

y por lo tanto queremos mostrar solidaridad porque forma parte de nuestra conciencia de nuestra exigencia ética porque la denuncia de vulneración de derechos humanos

nicaragua no es un país ajeno a nuestra realidad política en españa en dos mil dieciocho

multiplicando por más de quince veces las realizadas en dos mil diecisiete

fue violentamente contestada por el gobierno lo que provocó que las manifestaciones se extendieran por todo el país incrementándose entonces la represión violenta ocasionando

desaparecidos heridos y múltiples violaciones de derechos humanos nicaragua los nicaragüenses nos resultan familiares

en dos mil veinte tres mil setecientos cincuenta nicaragüenses solicitaron asilo humanitario

de nicaragua se han visto obligadas a salir de su país

de procedencia venezuela nicaragua colombia y honduras novecientos setenta y tres lo hicieron en bizkaia

en dos mil diecinueve la tendencia era a doblar esas cifras dije al principio que la iniciativa que tratamos pretendía ser altavoz y ejercer la solidaridad por eso la iniciativa presentada recogía fielmente la parte del informe del consejo de derechos humanos de

de su sesión celebrada a finales de marzo sobre la promoción y protección de los derechos humanos en nicaragua y que así se nos pidió por parte de los compañeros y compañeras nicaragüenses queremos ser útiles alzar la voz sumar apoyos para que nicaragua recupere derechos libertades para que nadie tenga que huir

y democráticas a finales de este año cuando están convocadas

iniciativa partidista hemos querido ayudar como lo quiere amnistía internacional cuando denuncia

a erradicar a cualquier precio el activismo y la defensa de los derechos humanos

en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en dos mil dieciocho parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido sin embargo afirman la pesadilla continua

continúa su relato señalando que organizaciones locales continúan denunciando como el gobierno utiliza al poder judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios

más de cien personas continuaban tras las rejas solo por ejercer

que decenas de personas detenidas por motivos políticos sufren de padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables al covid hemeretzi de acuerdo con testimonios recogidos por amnistía internacional

que podrían ser compatibles con el virus las pruebas son prácticamente inexistentes así como la atención médica o los cuidados sanitarios al salir de las prisiones

activistas excarcelados y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas como trabajar o estudiar y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad

incluyendo periodistas y quienes defienden los derechos humanos tengan que huir a otros países para resguardar su libertad y su vida las opciones eran la cárcel el cementerio

personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado afirman que en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre de dos mil veintiuno las violaciones a los derechos humanos que no se han detenido recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica

la comunidad internacional debe dar pasos contundentes para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a todas las personas que mantienen su lucha por una nicaragua

no nos detendremos en nuestra labor de denuncia hasta que el gobierno nicaragüense rinda cuentas por sus acciones y ponga un alto a las violaciones de derechos humanos veamos otro testimonio de otra organización humanitaria

tomada recientemente por la asamblea nacional de nicaragua

humanos dicen ningún contexto justifica la cancelación

estas medidas incrementan la indefensión de la ciudadanía en nicaragua

por parte del estado nicaragüense y nos aleja aún más de alcanzar una salida a la crisis que vive el país oxfam también ha mostrado su rechazo ante la suspensión de la misión del alto comisionado de las naciones unidas

manifestando que rechazan esta determinación del gobierno nicaragüense que no contribuye a la búsqueda de soluciones viables a la crisis política y social que vive el país

y conocer los responsables de los múltiples casos de violaciones de derechos humanos en los últimos meses

igualmente consideran que el acceso a la justicia reparación y garantía de no repetición son condiciones claves para una solución pacífica a la crisis por su parte otra organización humanitaria médicos sin fronteras relata que en dos mil diecinueve sus equipos en nicaragua ampliaron sus actividades para ofrecer atención médica psicológica o psiquiátrica a personas afectadas por la violencia política y social generalizada

a víctimas de episodios traumáticos vividos durante los conflictos armados

los testimonios de organizaciones humanitarias como puede apreciarse son

con los ya citados queda acreditada la situación al margen de ideologías o de sesgos gubernamentales que es un poco lo que hemos intentado

señorías las próximas semanas son decisivas para el futuro de los nicaragüenses si antes de finalizar el mes de mayo no se producen reformas electorales consensuadas para que las elecciones sean libres en igualdad de condiciones plenamente democráticas transparentes nicaragua seguirá en la oscuridad hay unas elecciones que pueden ayudar a recuperar derechos libertades democracia

que pueden aumentar la confrontación y la violación de derechos humanos sabemos y deseamos que la solución se dé

hemos planteado esta iniciativa actuando como altavoz y contribuyendo a la solidaridad con la mayoría social

nuestra intención no es hacer un debate político de confrontación entre nosotros sino sumarnos

este movimiento de solidaridad internacional para que ya

se pueda establecer un diálogo entre las fuerzas políticas en nicaragua entre el gobierno y la oposición

un punto y aparte a la situación de vulneración de derechos humanos y de penuria económica y social que está viviendo ese país para pasar a una situación más solidaria

desde el punto de vista político desde el punto de vista social y también económico

internationala da para amnesty international nicaragua es hoy en día el país que enfrenta una

en todo el hemisferio occidental y además a un nivel muy preocupante la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos

emitió ya en dos mil dieciocho un demoledor

acusándolo de cometer violaciones generalizadas de derechos humanos incluyendo

por parte de grupos armados bajo órdenes de ortega

de forma injusta fueron luego violadas y torturadas cuando estaban bajo custodia en edificios oficiales de gobierno

continuaba el informe ha forzado al exilio a miles de ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias

o después de manifestaciones brutalmente reprimidas que exigían del mandato de daniel ortega pero hace apenas dos meses

la misma oficina de la alta comisionada volvió

por la total falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas

asegura en este último informe que el gobierno no ha cumplido

y sigue después con una larga lista de reproches adicionales entre ellos critica la falta de garantías para el ejercicio

y asociación señala por otra parte que el gobierno tampoco ha establecido sanciones para quienes atacan o intimidan a los defensores de los derechos humanos ni tampoco ha tomado medidas efectivas para prevenir y erradicar la tortura asimismo subraya que el gobierno tampoco

a las normas internacionales ni ha hecho reformas de ley que puedan asegurar unas elecciones justas transparentes y democráticas si esto fuera poco

para investigar las violaciones de los derechos humanos ni la desarticulación de elementos y grupos

sigue dice en varios aspectos se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas totalmente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y en otra parte de este devastador informe

de la comisionada lamenta también la aprobación de una amnistía que allanó el camino a la impunidad de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos

le preocupa también que el gobierno siga negando la existencia

de lo que llama turbas violentas que participaron a la represión de las manifestaciones desde el año dos mil dieciocho nikaraguak

arautzeaz arduratzen den agintaritza creemos que solo habrá condiciones para unas elecciones democráticas primero con la inmediata

y con el pleno restablecimiento de las libertades

electorales para dar credibilidad al proceso electoral y superar la crisis que vive nicaragua desde hace años

del consejo supremo electoral la depuración del padrón electoral la observación nacional e internacional del proceso electoral y cómo no

muchas gracias presidenta buenos días a todos

saludar a la representación nicaragüense que hoy nos acompaña esta declaración que aprobaremos que

a favor del grupo parlamentario vasco popular ciudadanos no es una injerencia

es una necesidad democrática es un clamor en relación con la democracia en relación con los derechos humanos

sigue intentando mantenerse en el poder apoyándose en la represión en un aparato policial estatal que tiene como fin aplacar e impedir cualquier disidencia y más tras el baño de sangre ocasionado en las protestas de dos mil dieciocho

esa maquinaria letal del estado policial de los policías y de los paramilitares

las reformas electorales aprobadas para apuntalar su régimen

exige con riesgo de ser detenida perseguida o torturada la ayuda del mundo la ayuda de organismos internacionales de la unión europea

de otros países de estados unidos de otros países a los que intenta agarrarse esta oposición y encontrar desde luego el apoyo y tenemos que ser también nosotros los vascos y los españoles quienes a un pueblo hermano como nicaragua también tratemos de ayudarle en relación con sus pretensiones

pertinente este tipo de declaraciones como fue la de dos mil dieciocho por parte de esta cámara necesarias además el asedio contra la oposición es igualmente practicado contra la prensa

de reporteros que hablan cómo el acoso sistemático a la prensa pues es un hecho desde luego en nicaragua en este momento por parte del aparato estatal y represor así como contra los jóvenes los estudiantes que ya

y la propia iglesia católica también en el dieciocho que fue

reuniones en relación con la petición de libertades

muchos de los obispos de nicaragua siguen siendo acusados de terroristas y golpistas por haber

protestas en dos mil dieciocho y además haber sufrido muchos sacerdotes y muchos religiosos

ha ocurrido con miembros de la oposición con estudiantes o con periodistas

y más solo también en su propio país aunque rodeado de esa maquinaria estatal

de ese estado policial lo cierto es que impresiona en estos años leer los principales medios de comunicación de la prensa internacional en lo relativo a nicaragua

asusta la situación cómo la única que se consolida en ese país es una dictadura un estado policial

nacionales nosotros también nuestro grupo el grupo parlamentario popular ciudadanos hemos tenido contacto con miembros de la oposición nicaragüense la oposición democrática nicaragüense como también lo estuvimos en la legislatura pasada en dos mil dieciocho representantes de los estudiantes que nos visitaron y que hicieron que también este parlamento se pronunciase de una manera contundente en relación con lo que estaba sufriendo el pueblo nicaragüense y yo no me voy a repetir el señor prieto el señor aguirre ya han dado datos importantes en relación con

de huida de muchos nacionales nicaragüenses y nosotros con nuestra declaración es decir hago mía la declaración firmada por los grupos nacionalistas y socialistas hago mía la declaración constar la declaración seremos queremos ser útiles como

útiles a la defensa de los derechos humanos en nicaragua y también como ya se ha informado en los medios de comunicación ayer mismo es decir más de noventa organizaciones sociales políticas

nicaragüense pidieron ayer mismo al secretario

que exija la aprobación de reformas electorales en nicaragua

y justas en noviembre efectivamente ese apoyo esa búsqueda del apoyo en la oea a través de su secretario general pues es algo también que

miembros de la misma tienen que ser capaces de influir de una

en esa situación para concluir nosotros hemos simplemente hemos presentado una enmienda de adición a la iniciativa original

clara la enmienda de transacción a la proposición no de ley presentada por este grupo

aquel pronunciamiento que también fue de esta cámara y queríamos meter el inciso que espero sea aprobado

consideraciones y exigencias realizadas en la proposición no de ley aprobada por el pleno de la cámara de cuatro de octubre de dos mil dieciocho relativa a la situación de violencia en nicaragua no voy a recordar ahí están las actas

era una declaración clara de condena de los hechos de violencia acaecidos en aquellos meses de dos mil dieciocho

la vulneración del derecho a la vida el derecho a la reunión a la manifestación

exigíamos investigación expresábamos nuestra preocupación también

a que tomasen cartas en el asunto y desde luego lo que hacíamos básicamente es lo que seguimos haciendo ahora denunciar la grave deriva antidemocrática del presidente daniel ortega una deriva democrática

dos mil dieciocho ahora es cada vez peor además en relación con su afán de perpetuación en un régimen dictatorial y denunciábamos en aquel momento esa gran deriva antidemocrática del presidente ortega y de su gobierno

tiempos ciertamente duros y difíciles para la población de nicaragua eso decíamos en dos mil dieciocho está bien claro que

y nosotros no nos vamos a escapar de esa denuncia de la condena y de la exigencia en la medida que podamos de reformas democráticas

baina bi gaiei heldu beharko genieke quizás por una mirada excesivamente lejana a la situación se nos ha olvidado hablar de dos problemas fundamentales que también además de otros que ahora hablaré que son la situación vivida con los dos

aun afecta a miles y miles de personas ha supuesto pérdidas por más de ochocientos millónes de dólares y una caída del pib del seis coma dos por ciento hubiera estado bien que este parlamento

en ese sentido y luego también igual que aquí pero con los condicionamientos

del covid tanto en materia sanitaria como en materia de crisis socioeconómica y este parlamento perdió una oportunidad preciosa para pedir a los gobiernos y especialmente a la unión europea a que liberalizara las patentes para que países en vías de desarrollo

acceder a las vacunas de una manera más igualitaria igual que lo estamos haciendo en la unión europea

eso no ha existido en esta iniciativa ninguno de los dos grupos proponentes ni el grupo socialista ni el grupo nacionalista ha

hablar para intentar negociar una forma innovadora de entender el diálogo porque igual les sorprendía igual les sorprendía la posibilidad

en coherencia con las declaraciones que este parlamento ha aprobado con nuestro apoyo e incluso con nuestro impulso en muchas ocasiones y con la máxima de que la declaración universal de los derechos

puede presentar como contrato y compromiso con la sociedad respaldamos la labor de todas las personas activistas de todas las personas defensoras de los derechos humanos

su trabajo tal y como se recoge y se solicita en este último

unidas y de ahí nuestro primer punto de petición de que la actividad de los movimientos sociales de los movimientos feministas de los movimientos sociales por supuesto de la prensa y de cualquier otro movimiento que pueda haber que se quiera desarrollar en paz y normalidad sea protegido y se pueda hacer en

lo podemos decir lo mismo por supuesto para el activismo político además mostramos nuestro apoyo como no podía ser de otra manera en coherencia con lo que he dicho al principio con el punto cinco respecto a los derechos de los pueblos indígenas de naciones unidas del respeto al derecho de la consulta previa pero no solo el derecho

errefusatzen ditugu rechazamos cualquier detención arbitraria y cualquier uso desproporcionado de la fuerza aquí y en nicaragua en ese mismo sentido instamos a seguir las recomendaciones de la comisión interamericana de derechos humanos aceptadas por las partes en el marco

reclamando ese restablecimiento del diálogo y como decía además de nosotros también

también lo solicita la alta comisionada de naciones unidas para los derechos

en ese sentido saludamos la liberación de más de seiscientos veinte personas detenidas en el marco de la crisis del año dos mil dieciocho

por esa vía pensamos también que las comisiones de reconciliación pueden ser una buena vía para un diálogo entre las personas que piensan diferente y que junto a otros mecanismos pueden contribuir a los tres principios básicos que desde elkarrekin podemos izquierda unida establecemos

conflicto político que haya tenido además consecuencias

esclarecimiento de la verdad garantías de justicia y mecanismos de no repetición horrexegatik baita ere gure zuzenketan

zaizkiela para finalizar diálogo y elecciones este año dos mil veintiuno habrá elecciones en la república de

también y así lo volvemos a hacer instamos a las autoridades electorales a garantizar

electoral con la participación de distintos partidos y esperamos e instamos a que haya un acuerdo en ese sentido que contribuirá a un desarrollo normal de las elecciones para ello es imprescindible el reconocimiento

entre todas las partes la comunidad internacional tiene que ayudar en ese sentido dialogando el gobierno y dialogando con los sectores de la oposición fruto de nuestro compromiso con unas elecciones que se desarrollen y se ejerzan de una forma

nicaragua independientemente además del color político del gobierno de cada mi grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en el congreso de los diputados que se aprobó el veintiuno de diciembre instando al gobierno de españa y a la unión europea a contribuir en ese sentido ese es nuestro compromiso con nicaragua y con todos los países de la región de américa

que las sanciones establecidas en los últimos años contra determinados dirigentes gubernamentales y empresas públicas y privadas no ayudan mucho menos en una época de crisis sanciones que como ustedes me han oído hablar sobre otras sanciones a otros países son

unidas por tanto a la vez que pedimos diálogo inclusivo pedimos un acuerdo para que se puedan desarrollar las elecciones en

proceso se tiene que hacer así y así aceptaremos el resultado de dicho proceso de diálogo por supuesto y tal como todas las iniciativas que hacemos en ese sentido

y voto para decidir su futuro contribuyamos a que se haga

y en normalidad en la agenda de los derechos humanos como han podido comprobar aunque no han querido hacerlo nos podemos encontrar aunque en la agenda de la injerencia no gure partetik herriaren hitza hemen eta nik

y triste como indispensable escuchar sobre nicaragua

y hablar sobre nicaragua es tan doloroso y triste como indispensable eta horrela hasten genuen eztabaida hori eta bi urte beranduago

señora presidenta dos aclaraciones y un contraste porque en realidad mi papel hoy aquí

un socialista que tiene que defender una posición política propia sino que estoy ejerciendo de altavoz y de solidaridad con unos compañeros y compañeras nicaragüenses que están entre nosotros y que

nos han pedido que trajéramos aquí este pronunciamiento y por lo tanto no tengo

ni entrar en debates que ya lo hicimos el cuatro de octubre de dos mil dieciocho

la enmienda de adición del grupo popular no hay ningún problema todo lo contrario porque es efectivamente una ratificación sobre lo que ya hablamos en su día petición de votación por puntos tampoco hay ningún problema pero sí quiero hacer un pequeño contexto fundamentalmente con el señor martínez

hay que respetar la voz del pueblo es decir que tienen que ser los nicaragüenses los que

sería en este caso si estos señores y señoras que están ahí arriba y lo que ellos representan

si no son voz del pueblo si la voz del pueblo son los organismos gubernamentales efectivamente son los únicos que tienen que hablar

porque es la que está en desventaja en peor situación de vulneración de derechos humanos pues

la que nos dice que presentemos aquí una iniciativa de apoyo y solidaridad a lo que ellos están tratando de defender en el mundo entero a raíz

organización de naciones unidas y traemos literalmente eso es más cuando hacemos el contacto con los compañeros y compañeras nicaragüenses que fundamentalmente ellos nos hablan de las elecciones y entonces nosotros pretendemos hacer una cosa única y exclusivamente

no aunque ese es el elemento ahora más importante desde el punto de vista de

a esta situación que tenemos aquí queremos que sea

se ha valorado en el consejo de derechos humanos de la onu y esto es lo que traemos

la voz del pueblo traemos la voz de las organizaciones humanitarias traemos la voz

de organismos defensores de los derechos humanos y no traemos nada propio no traemos nada

del partido nacionalista vasco o del partido socialista sino de esa voz del pueblo nosotros

ella nos dijo hay posibilidades de llegar a acuerdo cierto que el señor aguirre yo habíamos dicho

podía haber algún acuerdo porque estaba bastante bien ordenada

aunque de acuerdo con lo que se nos había pedido que hiciéramos le pudieran faltar cosas como también ella lo ha reconocido esto quiere decir que

trabaja en un parlamento es que usted siempre se queja si no le llaman oiga parece que usted está

si cree que tiene posibilidades de acuerdo puede hacer el mismo recorrido solo que partiendo la iniciativa de usted qué es lo que pasa entre la enmienda de la señora etxebarrieta y su enmienda

por una cuestión de coyuntura de tiempo del momento en la

que esas elecciones deben de salir de un diálogo entre la oposición y el gobierno y en la suya en su enmienda lo que se dice con una

redacción un tanto alambicada es que es el gobierno y los organismos gubernamentales

si como con la cabeza me dice que no no se preocupe yo puedo leérselo durante una tarde las veces que quiera hasta que comprenda lo que usted ha escrito no tengo ningún problema pero esto es lo que viene y esto es lo que hace

que con usted haya acuerdo simplemente pero

si usted coge la enmienda de la señora etxebarrieta verá que hay bueno con sus matices una crítica clara bastante contundente a la violación de los derechos humanos y a las cosas que están pasando allí en contra de las libertades claro si se lee la enmienda que ha presentado usted sobre lo inevitable no puede decir que no pero todo lo que puede evitar lo evita y casi termina siendo su enmienda una adhesión a daniel ortega y compañía

pues tampoco se trata de hablar por hablar como he dicho en más de una ocasión

con su enmienda no podemos llegar a ningún lado entiéndalo eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

arazoak eta arrazoiak ez cuál es la situación política de nicaragua a finales de abril a seis meses de las elecciones

que era impensable hace seis meses ha logrado un pronunciamiento conjunto de toda la oposición exigiendo

y rechazando el proyecto de reforma electoral del gobierno qué es lo que pretendía la reforma impulsada por el presidente ortega pues

estimamos absolutamente inaceptables la primera la amenaza de impedir candidaturas después lo he señalado antes el veto para la observación nacional e internacional

a muchísimos partidos fuera de estas posibles elecciones de noviembre las limitaciones al padrón electoral

por la policía nacional para autorizar movilizaciones electorales eso es absolutamente

y también la incorporación a la ley electoral de reciente leyes represivas aprobadas en nicaragua

el pueblo de nicaragua el que debe de decidir su futuro y quién va a liderar el país pero para eso hace falta un mínimo de libertad de democracia y de ambiente

de los derechos humanos yo creo que debemos de reclamar rápidamente la implementación de reformas acordes con las planteadas por la onu incluso con las planteadas en el mes de octubre por la asamblea general de la

pero creemos realmente que este mes de mayo es crítico para concretar condiciones electorales apropiadas lo ha dicho el señor prieto

apremia y que nos tememos mucho que esto no se pueda acometer lo he dicho antes en euskera los que en mil novecientos setenta y nueve nos alegramos y mucho

y después los hijos cuarenta y dos años de dictadura hoy no podemos aceptar

a su antiguo enemigo que combatió y que ayudó a derrocar

estrictamente personal porque más allá de la deriva dictatorial yo creo que hace tiempo

o en la cárcel y no lo está porque gracias a su

logró durante años imposibilitar un juicio

y que después una jueza cómplice estableció la prescripción del delito sin tan siquiera convocar a las partes y si no

hija del actual vicepresidente de nicaragua y esposa

que le acusó de abusos sexuales cuando ella tenía menos de diez años y después de haberla violado en repetidas ocasiones únicamente por eso únicamente por eso

debería de serlo otra vez eskerrik asko aguirre jauna

sí intervendré desde el escaño con su permiso muy brevemente yo comparto no quiero alargarme lo manifestado

yo leía el otro día un artículo en el país el diecinueve de abril el callejón

y decía una reflexión también interesante hablábamos también de la presión internacional

en favor de los derechos humanos y de la democracia pero decía también que la presión que se pueda generar de afuera sin embargo no es suficiente si al interior de nicaragua no se constituye un bloque opositor sólido y homogéneo que reúna

dieciocho que acumula tres años de recesión económica y que según datos del banco mundial pasó de tener

en dos mil dieciocho a una contracción de tres coma nueve por ciento

esa misma institución estima la pobreza en cuánto ha aumentado

los golpes de los huracanes eta y lota y los estragos de la pandemia covid que tenemos que decir también en relación con este tema que

por el señor ortega en relación con esta cuestión así que yo creo que

para ver también la catadura del personaje y decíamos que había decenas de presos políticos es

la única salida de esta paradoja es la convergencia de fuerzas políticas que ahora se hace complicada

policéntrico y multisectorial esperemos que sea así muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

bai eskerrik asko señor prieto usted es perro viejo ya en política y yo tampoco tengo que se diga

demasiado larga pero usted ha querido caricaturizarme y

no lo ha conseguido porque no ha hecho ni siquiera el esfuerzo de escuchar los diez minutos y cincuenta segundos que he utilizado en mi primer turno

reconozco que aunque no esté en las mismas posiciones que mantiene el señor aguirre

que lo ha hecho porque por ejemplo no está hoy aquí presente pero con la portavoz en la comisión de derechos humanos

no tiene ninguna intención de hacerlo en este tema

conociendo un poco voy a resumir lo que he dicho en la primera intervención y además que se resumía en este informe de la alta comisionada de derechos humanos de naciones unidas que respaldamos y que

se recojan se apliquen por parte de las instituciones nicaragüenses eso lo primero lo segundo

se realicen unas elecciones libres y en condiciones de garantías

acuerdo pero mi solidaridad además es con todo el pueblo

el pueblo de nicaragua y de todos los pueblos del mundo no hacemos distinciones de primera

las vulneraciones de los derechos humanos pero no podemos hacer niveles ahora mismo

ha hecho y nosotros no hablábamos de que el gobierno

acaba de decir el señor aguirre del consejo supremo electoral que ahora mismo como le he explicado en mi primera intervención está en proceso de renovación y que como le he dicho espero que

de forma proporcional a través del diálogo y a través del acuerdo pero usted vuelvo a decir no ha querido escuchar nada de lo que le hemos

y para explicar nuestra posición de voto votaremos a ocho puntos que sí a tres nos abstendremos y por motivos de que

de acuerdo y votaremos únicamente que no al último

que la oea está totalmente desacreditada en américa latina para

naciones unidas por ejemplo otros organismos regionales pueden contribuir muchísimo mejor y sin injerencias al desarrollo de acuerdos para en este caso materializar unas elecciones en condiciones de libertad y garantías democráticas

el próximo semestre en nicaragua eskerrik asko eskerrik asko

planteamos a consideración de esta cámara una proposición no de ley relativa a una de

en esta cámara y que entendemos que es positiva para nuestro tejido empresarial hoy hemos venido a este parlamento a debatir esta propuesta

emprendedores etcétera que como todo el mundo sabe no están pasando su mejor momento han pasado ya

pero las reclamaciones que en ella se incluyen entendemos que siguen estando vigentes siguen estando vigentes porque la situación económica no ha mejorado y siguen estando vigentes

la situación digamos social jurídica y sanitaria que tiene toda nuestra sociedad a nivel nacional y también en euskadi pues está en una situación que lejos de mejorar sobre todo

pues no hay nada peor que la incertidumbre las restricciones a la movilidad evidentemente pues también afectan al tejido empresarial y dentro

como ya saben ustedes señorías siempre las pequeñas medianas empresas sobre todo

y otras cuestiones pues afectan especialmente a las empresas más pequeñas y a los emprendedores que pueden tener y tienen de hecho proyectos empresariales

a crear valor añadido riqueza y sobre todo

impuestos para poder financiar los servicios públicos que todos disfrutamos pero que en ciertas ocasiones y esta es una de ellas

lo están pasando ciertamente mal yo creo que desde los poderes públicos es conveniente que mandemos unos mensajes no solo de apoyo sino también mensajes destinados a las administraciones que tienen competencias en este sector

quizá podría haber medidas que podrían ser mucho más visibles mucho más quizá

acostumbra muchas veces a hacer algún presidente del gobierno

establecer propuestas concretas esta enmienda o esta perdón esta propuesta que planteamos nosotros

no me voy a extender demasiado sobre esta cuestión pero sí me gustaría repasar unos pequeños datos según un reciente informe del colegio de registradores el número de concursos

euskadi ha tenido el segundo peor comportamiento dentro de lo que es

y el número de concursos de acreedores pues ha aumentado del orden del trescientos veinticinco por ciento respecto del mismo mes hace un año es decir el incremento en euskadi ha sido

que en el resto de españa estas cifras yo creo que hablan por sí solas en euskadi se cierran más empresas que la media se cierran más empresas que la media

según el último recuento en lo que llevamos de año se han cerrado otras veintisiete empresas industriales ya no solamente sector servicios sino que se han cerrado veintisiete empresas

pues se cerraron noventa y siete y noventa y seis empresas también respectivamente es decir en conclusión

euskadi ha perdido seis de cada cien empresas industriales resulta evidente que la empresa

llevar a cabo el gobierno central las cortes generales los parlamentos autonómicos pero hay muchas como saben ustedes señorías hay muchas reformas que

y finalmente nunca se realizan veremos a ver ahora que nos van a condicionar la entrega

en qué queda la cosa ojalá seamos todos capaces de aprovechar esta oportunidad

para llevar a cabo estas reformas necesarias para que el tejido empresarial prospere porque la prosperidad del tejido empresarial supondrá la prosperidad de toda la sociedad

concretamente la propuesta que sometemos a la consideración de esta cámara intentado proponerla en términos relativamente digamos neutros o asépticos para que encontrara el máximo

una moratoria de las concretamente lo que se pedía básicamente es un aplazamiento de seis meses en el pago de la cuota

pero bueno establecer una moratoria un aplazamiento de medio año en el pago de la cuota de autónomos junto con otros

proposición no de ley dirigida a que este parlamento vasco haga un pronunciamiento dirigido a la administración general del estado hay otra propuesta similar en el congreso de los diputados

que se estará debatiendo y que se debatirá pero bueno nosotros creemos que es interesante que este parlamento vasco mande también ya

la situación de muchos negocios que pueden ser viables pero que desgraciadamente se encuentran en situación

económico financiero decía que va dirigida esta iniciativa

a las diputaciones forales bien tenemos otras estamos preparando otras propuestas destinadas concretamente a las instituciones vascas creíamos que podíamos comenzar de esta manera sobre todo destinadas fundamentalmente al tema de la cuota de autónomos que es algo que tienen que pagar todas las empresas

las vascas no estamos intentando evidentemente que las empresas no paguen impuestos sino que lo que se está intentando es establecer unos sistemas de pagos

es cierto y se podrá decir que algunas administraciones han establecido ya algunas medidas de este tipo pero también es cierto muchas moratorias están venciendo ya y por tanto parece correcto y sobre todo parece oportuno el volver a mandar un mensaje a las administraciones y concretamente en este caso

lo que es el día a día de las empresas de las que luego dependen otras personas y que sobre todo son las que contribuyen a la riqueza y al bienestar de todos hemos intentado

al presentar esta iniciativa se ha intentado un acercamiento con algunos de los

y también con los grupos que sostienen al gobierno aunque finalmente por distintas razones no ha sido posible llegar a un acuerdo

soto como a la señora berrojalbiz pues su interés sobre todo

quizá en otra cámara se llegue finalmente a un acuerdo en positivo sobre este punto me parece una lástima que perdamos una oportunidad como esta de llegar ciertamente a un acuerdo que puede ser amplio relativamente amplio

y mandar un mensaje claro sobre todo a nuestro tejido empresarial estamos con vosotros entendemos la situación entendemos lo que se está pasando mal y entendemos que es necesario que las administraciones se pongan también el papel que hace también el empresario el pequeño y mediano empresario el autónomo sobre todo y el papel que tiene social y económico

es un momento crítico desde el punto de vista político social y económico con frecuencia las personas no somos conscientes en ciertos momentos que hay ciertas situaciones específicas ciertos momentos concretos de la historia que son ciertamente críticos en el sentido de que son definitivos y van a suponer cambios muy importantes disrupciones como suele decirse en inglés que van a afectar

a muchos de los parámetros que hasta ahora veníamos manejando en el plano económico se entiende que es importante

y ayudar a mantener en la medida de lo posible lógicamente el actual sector empresarial aprovechar también estas medidas con otras que presentaremos en el futuro pero aprovechar estos momentos sobre todo para poner en valor

que paulatinamente podamos ir acordando entre las instituciones insisto en este punto en el punto de que creo que es muy importante que en este ámbito económico se pueda intentar llegar a los acuerdos más amplios que sean posibles

esta es una iniciativa más de la que vamos a ir presentando y apoyaremos toda iniciativa que surja de esta cámara y que entendamos que sea positiva para el sector empresarial decía que no parece por las conversaciones que he podido tener con distintos con algunos portavoces no parece que esta enmienda pueda salir adelante desde el punto de vista de la aritmética espero al menos persuadirles internamente en su fuero interno

podamos encontrar puntos de acuerdo a pesar de que los grupos más o menos me han hecho saber que no apoyarán esta enmienda nosotros sí que hemos visto

que ha presentado el grupo elkarrekin podemos es verdad que es una enmienda que parte

establecer aquí un primer paso que es el que proponemos nosotros que sería una moratoria inicial en el pago de impuestos lo que propone

el grupo enmendante en este caso es un esquema de ayudas

porcentajes de ayudas en función de la facturación que hayan alcanzado las empresas en años anteriores hombre es darle totalmente la vuelta a la iniciativa la mesa de esta cámara ha sido muy generosa con la

de la enmienda del señor soto bueno está bien y

suyos a pesar de que creo que es posible que no le haya conseguido convencer a usted para que apoye nuestra iniciativa pero algunos de los puntos que usted ha propuesto nos parece y me parecen personalmente que son interesantes votaremos a favor

se entiende y vuelvo a insistir que es importante que entre los grupos de esta cámara intentemos por todos los medios llegar a acuerdos aunque sean pequeñas transacciones mandando un mensaje claro al sector empresarial la enmienda que propone el señor soto

a los emprendedores un paquete de ayudas directas con matizaciones pero un paquete de ayudas directas más o menos en torno al setenta por ciento respecto de la facturación de la misma época del año anterior lo cual es algo muy positivo efectivamente

en este tipo de cuestiones se favorece además sobre todo una recaudación de impuestos mucho más transparentes se favorecen otra serie de cuestiones

vamos a apoyar como digo algunos puntos pero bueno en todo caso señor soto es una medida del gobierno alemán gobierno ordoliberal por excelencia siempre estado ordoliberal así que señor soto bienvenido al ordoliberalismo que junto con el neoliberalismo que todavía no nos ha explicado lo que es aquí pues yo creo que es el modelo en el fondo económico que tenemos en europa

y ya finalmente y ya finalmente

totalmente distinta que entendemos que se alejaba incluso de lo que era la esencia de la que se había presentado la unidad o la correlación con nuestra propuesta

que yo creo que hubiera sido una cosa muy conveniente el problema que hemos tenido también en parte y que nos ha impedido llegar a un acercamiento a un entendimiento con el gobierno a pesar de la buena voluntad que podíamos tener los portavoces viene porque

una pnl solamente puede transaccionar con los grupos que han presentado ya otra propuesta otra enmienda quizás sea una cuestión que podamos corregir en la reforma del reglamento

de la ponencia de reforma del reglamento y ya finalmente para terminar

una propuesta yo creo que vamos les animo a que en el futuro lo haga porque creo que podemos llegar a acuerdos y

tan interesantes que suele tener la señora berrojalbiz y poder a lo mejor incluso haber apoyado si no todo

así que nada espero que solicito la confianza de la cámara y espero sus argumentos previsiblemente en contra pero los espero con interés muchas gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna

en relación con la cuestión que tratamos la semana pasada respecto a la reducción

y me refiero con que parece el día de la marmota básicamente porque es una iniciativa calcada no parecida pero sí calcada a la iniciativa que se propone en el congreso de los diputados y la verdad es que

permítanme el comentario desde el cariño

amenazándonos con seguir trayendo iniciativas de este calado entiendo que lo hace con el propósito de impulsar y dar fuerza en esta cámara a lo que en principio ustedes plantean en el congreso de los diputados pero creo que sería más razonable en todo caso como usted bien ha dicho plantear iniciativas que toquen más la realidad

la aplicación del iva o el pago de las cuotas a la seguridad social no sea algo

que no se vive en nuestro territorio pero sí creo que en la medida en que nos encontramos en esta cámara sería oportuno que las iniciativas que planteamos

puedan realmente ser materializadas por parte del gobierno vasco que para eso estamos para impulsar iniciativas en ese sentido

ahora ya yendo un poco a la cuestión de fondo de la iniciativa decirle que creemos

la solución no es la panacea el hecho de aplazar el pago de impuestos creemos que no es equitativa en la formulación que ustedes hacen

el volumen de negocio es decir la pérdida de volumen de negocio no significa necesariamente si no está sujeta a otro tipo de condicionalidades necesariamente que vaya a

o a los autónomos que realmente lo necesiten es decir pueden haber tenido una bajada en el volumen de negocio pero eso no implica que necesiten o que requieran de un aplazamiento en el pago de los impuestos o sea creemos que ahí habría que ligar este aplazamiento

otras condicionalidades más allá de la pérdida de volumen de negocio creemos que además llega la medida o el planteamiento tarde ustedes dicen que lo propusieron hace tres meses y que por entonces

la economía sigue estando resentida pues que en cualquier caso

se han planteado se han puesto en marcha precisamente aplazamientos en el pago de impuestos por

a defenderlas pero por parte de las diputaciones forales se han planteado aplazamientos en el pago de impuestos entonces tampoco sé muy bien

tiene el traer la iniciativa luego por otro lado creemos que no es eficaz

que no es eficaz porque usted ha hablado de empresas en concurso de acreedores o ya en situación casi de liquidación y creemos que desde luego el que se aplace el pago de los impuestos no va a ayudar a que estas empresas salgan de la situación en la que se encuentran creemos que ahí

implicarse más por parte del sector público y en este caso de los gobiernos en relación con ayudas directas y es la razón básicamente por la que hemos presentado la enmienda a la totalidad y hemos planteado en qué supuestos creemos que sería necesario impulsar ayudas directas a empresas en este caso

mucha más necesidad que son empresas de nuestro tejido productivo pequeñas y medianas y no aplazamientos de impuestos por pérdida de volumen de negocio a la que

pagando impuestos de ahí la razón por la que hemos planteado la enmienda

que además respecto al tema de las ayudas directas como bien usted ha dicho hay países de nuestro entorno pero el propio

de coalición de españa ha planteado una línea de

de gran cuantía además una cuantía muy importante y creemos que ese es el modelo que hay que seguir en relación con el mantenimiento del tejido productivo porque creemos que esa es la fórmula y no ya digo el aplazamiento de impuestos

la panacea y la vía para que las empresas

adelante espero que en relación con los impuestos y se lo dije en la intervención de la semana pasada tengamos oportunidad en algún momento de verles a ustedes planteando un cambio estructural en el modelo impositivo pero que no favorezca siempre a los mismos en este sentido creemos que el tejido productivo

sostienen en gran medida la carga impositiva en relación con el impuesto de sociedades

corporaciones que se ven beneficiadas por ese ecosistema o esa

el gobierno vasco en este caso las diputaciones para ellas y en este sentido nunca les oigo nada y tal vez vaya siendo el momento de que podamos también hablar en este sentido tampoco les oigo hablar ustedes hablan del gobierno alemán tampoco les oigo hablar de la participación antes hablaba en una pnl anterior se hablaba de la participación pública en empresas no le oigo hablar del modelo de participación público

en empresas de alemania que también en este sentido es un modelo que creemos que habría que seguir por parte del gobierno

nuestra enmienda a la totalidad y lo que refleja respecto a la necesidad de ayudas directas al tejido productivo en lo que respecta a la suya es decir a la propuesta original no le vemos sentido tanto

además porque creemos que el contenido de la propuesta aunque en fin

por parte de diferentes instituciones pero creemos que no es la solución a los problemas ni desde luego la solución para aquellas empresas que realmente lo están pasando peor como las que están en proceso concursal y que en este sentido creemos que las vías debiesen ser otras en cualquier caso le agradezco como usted ha dicho en su parte final de la intervención

que ante una situación como la que vivimos en materia económica en materia de desarrollo económico y en materia impositiva

hacer el esfuerzo de intentar llegar a acuerdos creo que en ese sentido usted sí que lo hace también se lo digo más allá de que el modelo que ustedes plantean y el nuestro

parecido pero creo que sí que puede haber elementos en los que podamos encontrarnos

sí que creo que es positivo que

y por nuestra parte sí decirle que lo seguiremos procurando hacer así y esperemos que en lo sucesivo sí que alcancemos acuerdos

sino también con los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno y con el resto de grupos de la oposición pero ya le digo

sentido en cuanto a medidas que puedan realmente ser materializadas y aplicadas en euskadi y en este sentido creemos que esta medida no es así que se corresponde más a una agenda institucional que puedan tener ustedes prefijada en su organización política y que presentan esta iniciativa

en el congreso de los diputados y en todos los lugares donde puedan hacerlo y creo que no debiese ser así y más teniendo en cuenta la capacidad de autogobierno que tiene euskadi en este

gracias señora presidenta vox ha defendido desde los primeros días del estado de alarma del confinamiento de personas y del cierre de negocios

los daños irreversibles que se estaban produciendo catorce meses defendiendo ayudas directas relajación de la carga impositiva medidas menos restrictivas que aportaran algo de oxígeno a empresarios y autónomos que apenas podían respirar

nulo compromiso cero en soluciones cierre tras cierre y persianas bajadas eso es lo que nos encontramos durante todo este tiempo de agonía para miles de emprendedores

no parecen haberse tomado este asunto muy en serio negándose a las aportaciones

parlamentarios aquí representados e imponiendo un modelo de gestión de la pandemia y de sus consecuencias que han condenado al cierre a miles de negocios a los que no se ha dado ni una sola oportunidad recuerdo cuando se no cobrar la cuota de autónomos justo en el mismo día en que se cobró dicha cuota

tiene su punto terrible y lo tiene porque son miles los emprendedores que hoy lo han perdido todo los que ya no pagan tributos porque no tienen un negocio que gestionar

quizás aprobemos instar al gobierno central a que haga algo

lo que hoy aquí se plantea no sé esos aquí te doy yo para que tú me des a mí a cambio aunque ahora mismo el pnv poco tiene que ofrecer a un señor sánchez al que las cuentas no le salen de ninguna manera

haga lo que quiera y lo que crea conveniente cuando hasta ahora ha sido no os mováis que me estropeáis los datos oficiales por otro lado la enmienda de podemos

he de decir que su enmienda tiene sentido es más casi debería ser un enfoque compatible con lo que plantea la coalición pp ciudadanos pero y el pero es muy importante

mucho dinero y ni este ejecutivo ni el suyo en madrid disponen de los fondos necesarios recordarles que españa es líder mundial en deuda pública

pero claro poner los pies en el suelo podría aguar esta nueva intentona de marcar perfil aunque sea para mostrar su apoyo a esos empresarios a los que han negado constantemente sin pudor

y eso es solamente una parte del rosario de halagos que ustedes y su líder les han regalado

de un goteo constante e imparable de cierres de comercios sabiendo que la situación era dramática sin incluir esta entre las prioridades del gobierno un pleno más un punto del orden del día más para marcar perfil y poco más y empresarios y autónomos necesitan actuaciones acción ayuda constante

no van a mantener abiertos los negocios que hoy peligran ni por supuesto van a ayudar a que reabran sus puertas aquellos miles que ya han cerrado por quiebra eskerrik asko

numeremos la batería de medidas que ha puesto en marcha tanto el gobierno central como el gobierno vasco para el sostenimiento del empleo y la economía en esta crisis generada por la pandemia

y también necesario puesto que la respuesta del gobierno para proteger al colectivo de las y los trabajadores autónomos desde el estallido de la pandemia ha sido de lo más extensa

la protección que han tenido los autónomos en esta crisis de la covid ha permitido mantener el empleo como indican los datos de afiliación al régimen de autónomos en el mes de marzo de dos mil diecinueve se situaba en tres millónes doscientos cincuenta y cuatro mil setenta y ocho y en el mes de marzo de dos mil veintiuno ascienden a tres millónes doscientos setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés es decir

y ha sido la articulación de la prestación por cese de actividad como una prestación mensual extendida en el tiempo

una de las medidas que más han ayudado y que han sido prorrogadas hasta el treinta y uno de mayo gracias a un nuevo acuerdo con las asociaciones más representativas

de los que a euskadi le han correspondido doscientos veintitrés millónes de euros asimismo se han prorrogado la prestación extraordinaria por cese de actividad las ayudas por bajos ingresos la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y la flexibilización

de actividad para el sector de la hostelería por otra parte tenemos las moratorias y los aplazamientos de las cotizaciones sociales y del pago de deudas a la seguridad social

la seguridad social va a seguir permitiendo los aplazamientos de cuotas de los trabajadores autónomos afectados por el coronavirus estos profesionales deberán solicitar el aplazamiento durante los primeros diez días de cada mes y podrán pedir aplazar las cuotas de enero febrero y marzo de este año

todas estas medidas tienen como objetivo efectuar los ajustes necesarios para mantener las medidas de apoyo

veintinueve de septiembre y que se siguen considerando imprescindibles

en cuanto a materia tributaria una de las últimas medidas puestas en marcha por el gobierno en la disposición adicional tercera del real decreto ley cinco barra dos mil veintiuno

así como ciertos aplazamientos se incluye la posibilidad de aplazar las declaraciones del primer trimestre en ese sentido los autónomos que quieran aplazarlas podrán hacerlo en seis meses sin tener que abonar intereses de demora

cabe destacar otra medida de tipo fiscal muy importante como es la adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos por su parte las diputaciones forales de álava bizkaia y gipuzkoa

a los contribuyentes más afectados por las consecuencias de la pandemia entre las que destaco hoy

que son los autónomos estarán exentos de abonar el pago fraccionado del irpf correspondiente al cuarto trimestre de dos mil veinte que se abonaba normalmente en el mes de enero

las rentas correspondientes a ayudas extraordinarias otorgadas por las administraciones públicas a los autónomos como consecuencia de su afectación

y establecen un régimen de aplazamientos excepcionales sin garantías ni intereses

y deberá ingresarse mediante su fraccionamiento en seis cuotas mensuales del mismo importe la última medida además ha sido la introducción de nuevos incentivos fiscales

a negocios que se han visto especialmente perjudicados por la crisis de la covid por último para terminar también recordar que junto

y otras moratorias para las devoluciones de los créditos o el pago de los alquileres en el caso de autónomos o personas vulnerables recientemente se ha aprobado la nueva línea de ayudas directas a autónomos

dotada con siete mil millónes de euros que tiene como objetivo que las comunidades autónomas

por la pandemia para el pago de las deudas contraídas por las empresas desde marzo del dos mil veinte por todo ello

que ha presentado su grupo ya que plantea una solicitud de medidas de moratorias y aplazamientos

y en todo caso entendemos más adecuado solicitar que se sigan prestando mientras la situación financiera del tejido empresarial esté afectado por esta crisis

bizkaiak aplazamiento extraordinario del pago de impuestos porque es que

se aprueba un aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de trabajadores autónomos microempresas y pequeñas empresas y el estado lo ha comentado la señora pérez en el real decreto siete barra dos mil veinte

y con la carencia de intereses previamente explicada que creo que no merece la pena que vuelva a explicar baina zer daukagu hemen gainean

nos trae una propuesta con una visión única y exclusivamente estatal usted ha dicho en su primera intervención que en el congreso de los diputados se había presentado algo parecido no parecido no exactamente lo mismo con la única diferencia que evidentemente no ponía parlamento vasco no hacía ese viaje del parlamento al congreso era el congreso el que instaba al gobierno español pero exactamente lo mismo y con fecha veinticinco de enero la presentó el grupo de ciudadanos en el congreso de los diputados eso sí todavía no ha pasado a debate esa proposición no de ley

a debate es más es la misma propuesta que llevó el grupo de ciudadanos en un debate en la comunidad de la rioja que es así se llevó

porque además es muy curioso que en ese propio debate porque en la comunidad de la rioja no es grupo partido popular ciudadanos sino partido popular por un lado

y en ese propio debate pues también es curioso ver cuál es el posicionamiento del partido popular

allí la representante del partido popular contestó a su compañero o compañera de grupo de partido

claro esto pasa cuando tenemos aquí un grupo partido popular ciudadanos y en el estado en el congreso funcionan cada uno por su cuenta mire yo le tengo que decir una cosa señor gordillo usted otra vez y lo insisto

de estado única y exclusivamente del estado y no ha hecho ni mención ni ha tenido en cuenta la situación económica ni jurídica de la comunidad autónoma vasca usted una vez más se ha saltado el concierto económico literalmente porque parece que el concierto económico a su grupo no le interesa y nos habla de los impuestos

cuando estamos hablando de pymes micropymes y autónomos que pagan los impuestos cada uno en su hacienda foral entonces bueno yo la verdad es que estaba acostumbrada a otra visión del partido popular en esta cámara

en falta a alguno eh estaba acostumbrada a otra visión por lo menos

acomodaban las propuestas del congreso a la situación de la comunidad autónoma vasca en este ámbito y si está el concierto económico de por medio por lo menos tengámoslo en cuenta

solo además es que sinceramente es que su propuesta yo la leí y dije debo de estar en una comunidad autónoma de régimen común y no me he enterado y no me he enterado

palabra por palabra la habían presentado en otras comunidades autónomas estas sí de régimen común entonces

sus debates en el congreso de los diputados a la cámara vasca pero esto es la cámara vasca y habrá debates

pero por favor adecuémonos a la realidad de cada territorio y esta propuesta no está adecuada a la realidad de la comunidad autónoma vasca en temas fiscales y podemos entender lo he dicho en euskera podemos entender que el retraso del pago de la seguridad social del pago de autónomos puede ser un alivio en ese momento

de tesorería claro que sí y retrasar el pago de impuestos claro que sí

en aquellos ayuntamientos en donde hemos podido realizarlo pero por favor

vasco popular ciudadanos pretende aliviar la situación financiera de las empresas vascas instando medidas al gobierno de españa instan al gobierno de españa a un aplazamiento tributario entre otras medidas a fin de dar pulmón financiero a las empresas vascas

en la justificación de su iniciativa una redacción un tanto paradójica ya se lo decía

que la modificación o aplazamiento tributario en el estado no aliviará la situación financiera de las empresas vascas bueno hay alguna excepción por volumen de operaciones en concierto económico que sí que podría afectar vale alguna excepción

por lo que cuál es el objetivo de tratar esta solicitud de aplazamiento tributario en este parlamento cuando primero

podría entender que al igual que elkarrekin podemos izquierda unida lo hace con su enmienda se inste al gobierno vasco a establecer ciertas medidas sin embargo ustedes traen aquí un debate muy interesante en cuanto a las medidas que proponen no diré yo que no pero mal direccionada en cuanto a que las beneficiarias no serán directamente o principalmente ni la ciudadanía vasca ni

creo que no se debería menospreciar las capacidades de nuestras instituciones vascas en materia fiscal llevando un debate foral al estado lo que me hace pensar que detrás de esto detrás de todo esto

es la posición de cada uno de los grupos sobre las competencias y el autogobierno vasco de hecho tenemos pendiente un debate en esta cámara sobre la recentralización fiscal presentada por su grupo en el que asumo que por coherencia con su programa de coalición se posicionarán a favor de nuestro autogobierno pero como dice el refrán del dicho al hecho

segundo respeto hacia las competencias y me explico no se entiende que desde el parlamento se le diga al gobierno español lo que tiene que hacer con sus deudas

le diga qué hacer con sus deudas y tributos creo que deberíamos dejar de invadir competencias y deberíamos dejar gestionar a cada cual lo que le corresponde sin perjuicio de que desde cada grupo parlamentario vasco impulsemos y propongamos al gobierno vasco las medidas que consideremos como en este debate ya lo he dicho antes lo ha hecho desde su visión

y por tanto no tengamos posibilidad de acordar nada por la dirección dada en la enmienda por el grupo elkarrekin podemos

ya que estábamos dispuestos a votar a favor de dicha propuesta de transaccional seguro que tendremos más ocasiones bien para hablar del modelo de ecosistema bien de la atracción y del arraigo de las empresas estratégicas de las distintas fórmulas sobre los fondos europeos

que hoy aquí se han citado tercero tanto el gobierno de españa

ya lo han anticipado todos los portavoces que me han precedido pero simplemente por reforzar y justificar la posición que mantenemos

por la parte foral y en su ámbito competencial que es el fiscal nos encontramos con medidas como la flexibilización de los requisitos

financiera y fiscal de las empresas vascas con aplazamientos tributarios sino también flexibilizando ciertos requisitos en los incentivos fiscales

también eliminando los pagos fraccionados del irpf de autónomos que tampoco se ha comentado

y ampliación de los supuestos de aplazamientos que no precisarán de garantías y respecto a las medidas estatales que

critique las medidas establecidas pero me resulta llamativo que existiendo las

traigan ustedes aquí a este debate tan circunscrito a asuntos fiscales y de seguridad social el real decreto ley el último del doce

que recoge una ampliación de los aplazamientos de pago de seis meses para deudas generadas hasta treinta de abril

que en su disposición final cuadragésimo tercera preveía la moratoria del pago de las cuotas a la seguridad social por tanto

pero señor gordillo todavía no hemos podido reflejar nuestro voto en madrid sobre esta iniciativa y sí sobre esta misma

una vez más una réplica de la ya presentada por el congreso por ustedes pero en esta ocasión con una diferencia

podrían haber esperado al resultado de la votación en la institución donde corresponde el debate y donde todos los grupos parlamentarios de esta cámara

adaptar su iniciativa a la particularidad foral pero veo que no actúan de este modo con lo que

a ver cuál es el interés particular en abordar hoy aquí un debate que está pendiente de sustanciarse donde corresponde

todos y todas somos conscientes de lo que está sufriendo nuestro tejido empresarial de la crisis por la que atraviesa

tengo ninguna duda y creo que todos los grupos parlamentarios compartirán mi conclusión el gobierno vasco las diputaciones forales y este grupo parlamentario los nacionalistas vascos hemos acompañado a nuestro tejido empresarial en el pasado les estamos acompañando ahora en esta fase de resistencia

iré repasando un poco las distintas cuestiones que me han ido dirigiendo con la pena interna de que se han tomado ustedes mucho tiempo

qué se yo o repetir las acciones que distintos gobiernos y administraciones pueden estar llevando a cabo

y poco en presentar alguna propuesta alternativa que me habría encantado de verdad discutir una pena pero bueno otro día será

mi intención real con esta iniciativa era simplemente encontrar un punto en el que creó por

que podía haber un mínimo punto de encuentro yo creo que es muy positivo que vayamos alcanzando acuerdos importantes y transversales en materia de economía creo que es absolutamente

para avanzar en esa senda y creo que desgraciadamente pues lo hemos desaprovechado ojalá los otros grupos que han criticado con distintas razones esta propuesta hubiesen presentado

llegar a un acuerdo que era mi intención no creo que sea una iniciativa que haga daño más bien todo lo contrario es

una solución a todos los problemas que tengan las empresas en dificultades pero bueno

es un añadido más que en todo caso no es incompatible con otras medidas cada grupo pues se ha esforzado mucho en presentar

igual puedo compartir incluso algunos elementos pero desgraciadamente creo que hemos perdido una oportunidad hoy en este parlamento

que al menos en materia económica que insisto al igual que en materia sanitaria estimo que es absolutamente imprescindible una senda insisto en este consenso al menos económico

señor soto no voy a decir que me ha dolido pero en fin yo intento

el presentar iniciativas iguales o similares en distintos parlamentos que eso no se hace si por algo se caracteriza su partido

esta frase quedará aquí grabada en el diario de sesiones a ver

yo no creo que este parlamento vasco sea un sitio no cualificado para comentar estas cuestiones y además

o sea que el parlamento vasco está sometido al congreso de los diputados

sí que puede haber puntos mejorables evidentemente pero insisto la iniciativa

llegar a acuerdos llegar a consensos y quizá entre todos poder avanzar juntos en esta cuestión como le decía yo antes al señor soto

me parece bueno pues que vote en contra de la iniciativa en fin pues ya lo explicarán sus grupos

yo sí creo que toda iniciativa en positivo debe ser tomada en consideración seriamente al margen de que parlamentariamente se critiquen ciertas iniciativas en este caso critican ustedes la mía pero bueno yo creo que la suya tiene aspectos que son positivos

creo que es el buen camino en cuanto a la señora

ha ido repasando todas las medidas del gobierno etcétera bien bien está bien

pero insisto si somos incapaces de llegar a un acuerdo en algo tan simple como lo que se estaba proponiendo aquí hoy

yo creo que llegar a acuerdos mayores en materia económica va a ser muy complicado va a ser tremendamente complicado me ha encantado el piropo de la señora pinedo

pero hombre creo que iba un poco por otro lado no creo que me intenta criticar el tema este del reparto competencial y tal

que sean convenientes y luego nada finalmente solamente quiero agradecer en todo caso el debate

que podría haber servido de botón de muestra podría haber servido por lo menos de un primer paso para llegar a acuerdos mayores si no hemos conseguido ponernos de acuerdo en algo así

sorprendente es verdad que no está la señora martínez pero que una formación política que ha votado en contra

de los erte de la prestación por cese de actividad de autónomos

del plan de ayudas directas planteado por parte del gobierno de españa que esta formación política a decir que no defendemos al tejido productivo ni a los autónomos ni a quienes peor lo están pasando en la pandemia

resulta absolutamente hipócrita y cínico y quería decirlo se comentaba que de dónde se saca el dinero para todo esto es que es el momento de sacarlo porque sino

estas son medidas paliativas que tienen un sentido preventivo si no actuamos ahora nos endeudamos y hacemos uso del gasto público perderemos una década como la hemos perdido

por tanto sí ahora es el momento de aplicar estas medidas de gasto público y de impulso del tejido productivo señor

respeto al marco competencial yo la verdad es que no lo dudo pero creo que trayendo estas iniciativas aquí en fin incurre en una contradicción y es que usted seguro que tiene un respeto muy profundo respecto

características aquí lo contradice absolutamente lo contradice absolutamente esto debiese ser algo tratado y abordado de los diputados y en su caso si usted quiere replantear el marco competencial en este sentido hágalo pero hablemos de eso no hablemos de iniciativas que tienen que ser

y que por tanto aquí vamos a un debate estéril en el que nada de lo que saliese adelante podría ser materializado en cualquier caso le agradezco el voto favorable

con ayudas directas de este calado formaciones políticas como el pnv y el partido socialista que le acompaña también lo hagan en algún momento en cualquier caso ya digo le agradezco el apoyo a nuestra enmienda y la verdad es que

nuestra enmienda a la totalidad hubiese sido realmente la pnl que se debatiese hoy

que usted quiera buscar acuerdos transversales porque tampoco le conozco lo suficiente y estoy segura de que los busca pero en temas económicos hay

en cosas muy importantes que en este parlamento se ha debatido muchas veces y

con euskal herria bildu que hubiéramos presentado enmienda sabe qué pasa que hay propuestas que cuando uno las lee dice de verdad voy a presentar una enmienda

yo cuando leí su propuesta y se lo he dicho en mi primera intervención dije de verdad

que puede ser pero que no la han llevado a debate y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos me huelo que no van a llevarla a debate porque hoy es veintinueve de abril entre ponte bien y estate quieto seguramente en el congreso de los diputados no la lleven a debate

si se puede debatir en el congreso se puede debatir aquí no me diga

usted que el marco competencial está absolutamente

respeta y tal si yo sus palabras las puedo creer este texto este texto no está acorde a la situación competencial de este territorio que me hable de aplazamientos

hay algunos casos muy concretos habas contadas y no son las pymes de mi barrio ni el autónomo de mi barrio señor

las excepciones que hay que puedan tener implicación

perfectamente entonces a mí trampas con la bolita

entonces por favor si queremos hablar de impuestos hablamos de impuestos sin ningún problema

no hay ningún problema pero vamos a hablar en el marco en el que tenemos que hablar

en el que nuestras haciendas forales son competentes y son las que han tomado las decisiones

y otras que seguro que no me gustan porque le digo que hay muchas que no me han gustado ni a mí ni a mi grupo y lo hemos dicho en las juntas generales pero

y por favor no lleve adelante su amenaza de traer todas las propuestas del congreso de los diputados porque se va a encontrar lamentablemente en esta situación

empiezo donde he acabado mi primera intervención el partido nacionalista vasco

aunque peleemos por un mayor autogobierno económico financiero nosotros en euskadi debemos hacer nuestro camino y forjar nuestro futuro

reforzando nuestro autogobierno y teniendo nuestro espacio en europa y eso es lo que estamos haciendo desde el partido nacionalista vasco

para incluir ciertas exenciones a ciertos bienes no solo a sanitarios

y por tanto ante esta heterogénea crisis que afecta y seguirá por desgracia afectando a nuestra sociedad

ayudarles en esta difícil situación y ejemplo de ello es el esfuerzo realizado con el programa covid con ayudas en dos mil veinte por importe de ochocientos cincuenta millónes de euros y de quinientos cuarenta y dos millónes este dos mil veintiuno un total de

etcétera ayudas para esta fase de resistencia pero también planes y programas

y como ejemplo reciente con el plan de emprendimiento dos mil veinticuatro que contempla el reto de consolidar un ecosistema atractivo para aportar valor y calidad de empleo con una inversión proyectada de trescientos noventa millónes de euros

también nos esforzaremos para que el gobierno de españa implante medidas en beneficio de la ciudadanía y de nuestro tejido productivo pero debatiendo y proponiendo donde corresponden como lo hace en nuestro grupo en madrid sin invadir competencias eta hau da bidea lan egiteko bidea

por puntos la de podemos

vale nola cómo pueden agrupar los tres primeros puntos y luego
el cuarto aparte bozkatuko dugu

master spain cune bodegas faustino bodegas de los herederos del marqués de riscal eta araex

cada vez más tierra al servicio de unas pocas grandes empresas lo que está sucediendo es pura especulación

me gustaría recordar unos datos que también mencioné en mi interpelación de diciembre doce de los quince ayuntamientos de la comarca están perdiendo población en samaniego trece coma cuarenta y ocho por ciento en villabuena eskuernaga nueve coma cuarenta y uno por ciento

se están cerrando las escuelas de los pueblos la población cada vez más envejecida no hay relevo

de los hoteles de lujo por qué qué es lo que falla a nuestro entender es la falta de esperanza la gente de la comarca no de futuro no ve una manera digna de ganarse la vida allí

ha descendido en los últimos años en los datos definitivos de los precios medios ponderados de ventas de vino a granel de la cosecha de dos mil diecinueve en el estado

veinte coma cuatro por ciento en el tinto dieciséis por ciento en el rosado y diecinueve coma siete en el blanco argi dago upategi txikien eta familia upategien arrakastak

por eso hemos intentado lograr el mayor acuerdo posible y me gustaría agradecer la disponibilidad

de facilitarnos esa labor eskerrik asko finalmente hemos pactado una transaccional con los grupos que sostienen al gobierno y con podemos ezker anitza con el compromiso de que las cosas de un giro de que se destinen los recursos necesarios propios o no

no podemos dejarles en la estacada gure oinarrizko mozioan

estamos ante un acuerdo que la verdad es que para nuestro grupo parlamentario es muy importante

algunas dudas que espero que algunos de los grupos que

aclararnos pero en cualquier caso nos parece que es un acuerdo importante y en este sentido

sobre todo al grupo proponente que en este caso ha sido eh bildu la capacidad de tejer en este sentido acuerdos

querría incidir en una cuestión que ya se ha mencionado y que para nosotros y nosotras es muy importante y tiene que ver con la diferenciación que existe en el sector con respecto a las bodegas familiares o a las bodegas pequeñas y medianas con respecto

marcas a las grandes bodegas en este sentido sí que decir que en el primer punto de la moción transaccionada se dice que hay que poner lo que representa como agente económico social y fundamental para el desarrollo rural el y también como elemento

especialmente entiendo las bodegas familiares esto en contraposición creo

de cohesión territorial y también de vinculación con la identidad anclada en el territorio

bodegas pues por la capacidad de producción enorme de la que disponen las marcas y las comarcas pues tienen mayor capacidad adaptarse en sus ofertas a diferentes requerimientos o etiquetados mientras que las bodegas pequeñas y medianas no tienen esa oportunidad

bodegas no ejercen esa función social de la que hablaba mientras que las bodegas pequeñas y medianas sí y en este sentido en lo que respecta a la acción del gobierno vasco y de las diputaciones lo fundamental en este caso sería atender a las necesidades de urgencia que tienen las pequeñas y las medianas porque las grandes ya de por sí por su cadena

salen del paso ante la difícil situación que vivimos en pandemia y también sin necesidad de este momento coyuntural

por su propio camino tienen el recorrido hecho mientras que las pequeñas y las medianas no y en este sentido creemos que ayudas que además luego están condicionadas a su evolución

son la vía de solución y la fórmula para sostener este tejido productivo sino que creemos que la fórmula son las ayudas directas nosotros en la enmienda

que planteábamos hacíamos referencia fundamentalmente al real decreto cinco barra dos mil veintiuno que se refiere

gobierno de españa y a la oportunidad que existía de hacer uso de ellas en relación con este sector pero parece ser que se dice que desde las instituciones tanto desde el gobierno vasco como desde la diputación existe capacidad para hacer frente a esta coyuntura y a esta

a través realmente de ayudas directas porque ya digo que en el segundo punto se dice analizar una línea específica de subvenciones directas bueno esperemos que de ese análisis

acabe la conclusión o se llegue a la conclusión de que

una línea directa y específica de subvenciones especialmente para las pymes y micro empresas luego por otro lado también decir que la situación de las bodegas de las pequeñas y medianas

es crítica en relación también con las ayudas europeas y con el nuevo modelo de pac y también respecto y se daban los datos a la percepción de ayudas no directas

en tanto en cuanto estas van fundamentalmente dirigidas a las

básicamente porque están ligadas al stock y

de almacenar mientras que las pequeñas y medianas no y luego por otro lado en este momento de pandemia las pymes y las microempresas que

no han tenido capacidad de hacer uso de su producto de colocar su producto en el mercado mientras que las bodegas grandes que venden a grandes distribuidoras en este caso a supermercados oportunidad de colocar el producto en el mercado es más han tenido mayor capacidad de venta en este momento de pandemia en cualquier caso por otro lado también creemos que

estos productos y de apoyar la digitalización de las empresas del sector también porque creemos que lo que tiene que ver con el relevo generacional

esta digitalización y esta mejora técnica del sector pero que tiene que venir acompañado por el gobierno vasco o por el impulso y liderazgo del sector

dificultades evidentes para poder profesionalizarse en este sentido y aquí el gobierno vasco y las diputaciones tienen que poner esfuerzos e impulsarlo pero en cualquier caso nos parece acertado que se hayan incluido estos puntos y sin extenderme mucho más decir que bueno pues agradecemos como decía al principio la voluntad de acuerdo que en este caso desde esta cámara la necesidad de apoyo a las pymes y microempresas de las bodegas de la rioja alavesa y que creemos que estos acuerdos se materialicen en cuestiones concretas e iniciativas concretas y especialmente lo que para nosotros es muy importante que tiene que ver con líneas específicas de subvenciones

gracias presidenta consejera señorías buenos días

asunto del apoyo a las pequeñas y medianas y familiares bodegas de

al gobierno vasco que se implique que se implique en exigir también al gobierno central fondos para este tipo

pequeñas y medianas bodegas que las pelee también en el ministerio de agricultura o donde proceda pero lógicamente además hay que hacer cosas aquí y ese es el plano en el que nosotros nos movemos rioja alavesa

para álava por supuesto y para el conjunto del país vasco y en esta declaración nosotros entendemos que también en lo que es la

y la propuesta original desaparece también un actor esencial

de denominación de origen calificado de la rioja como actor

tiene que colaborar en el espacio que lógicamente pues las instituciones el gobierno la diputación pues se establece pues también el consejo es un actor importante el que agrupa

a rioja alavesa a rioja alavesa también como fundadora de ese consejo

bildu y pnv tienen su particular proyección en contra del consejo regulador pero en cualquier caso nosotros entendemos que es algo es un actor importante

que todas las actuaciones merece la pena hacerlas bajo el paraguas de la denominación rioja

ya conocido no es nuevo pero también de partida y también

lo importante es ayudar de verdad ayudar de verdad efectivamente reconocer la importancia que tienen las pequeñas y medianas bodegas de rioja alavesa pero también nosotros lo habíamos dicho y enfocado como sería

a pequeñas y medianas bodegas que permita ayudas directas a fondo perdido para compensar las pérdidas por la pandemia y por la situación que ha generado

que han sido en torno a treinta y cinco cuarenta por ciento

en dos mil veinte en relación con esta cuestión o sea que no es una cosa que nos saquemos de la manga sino que está

en trescientos setenta y doscientos cincuenta millónes de euros la facturación de los viticultores descenderá entre cuarenta ochenta millónes de euros y eso es

ayudar hay que establecer ese plan que nosotros entendíamos específico de ayuda a esas bodegas

para rioja alavesa no concuerda con los cálculos del ministerio de agricultura que ha expuesto para el conjunto de rioja una caída de facturación del ocho coma cinco por ciento y eso no es así tal y como se ha hecho

en nuestra tierra es decir ya que de las cuatrocientos bodegas inscritas en el consejo regulador de origen rioja más

en rioja alavesa y de estas alrededor de doscientos son pequeñas y medianas bodegas

por reducción de ventas entre el cuarenta y sesenta por ciento por aumento de costes fijos por tener que albergar entre dos o tres cosechas de uva que eso también incrementa mucho esos costes aumento de costes

habida también en dos mil veinte pérdidas importantes también en muchas de esas bodegas por la vertiente turística

en el que confluye su actividad vitivinícola y por estas cuestiones

han sido de mínimos al sector vinícola de diciembre

yo creo que es importante dar un paso más tener un poco más de ambición en lo que se le puede exigir al gobierno como igual tenía

inicial pero que luego se ha rebajado nosotros sí que entendiendo ese reconocimiento explícito a la pequeña y mediana bodega de rioja alavesa nosotros también entendíamos que ese plan de ayudas se tenía

compensar las pérdidas y lógicamente las acciones

con el esfuerzo que se puede hacer juntamente con los actores en colaboración con la diputación en colaboración

regulador en toda esta cuestión efectivamente esa era

que nosotros trasladábamos yo creo que la enmienda de transacción que tengo que agradecer a la señora etxebarria también

eran las propuestas o de cómo han estado nosotros no nos hemos sumado definitivamente a la transacción pero creo que la enmienda de transacción se queda un poco corta en relación con lo que era

es decir que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en colaboración con los agentes implicados analice el análisis ya está hecho el análisis lo ha hecho

en su caso el ministerio lo han dicho muchos actores lo ha hecho el consejo regulador lo han hecho las otras asociaciones

esa sería la expresión ponga en marcha esa línea específica de subvenciones analizar ya está hecho el análisis

hay otras cuestiones en relación con fomentar la diferenciación

ya se ha puesto en marcha en el consejo regulador de rioja hace cuatro años y funciona bien actualmente permite diferenciar por procedencia es decir vino de rioja alavesa vino de municipio viñedo singular vino de parcela

bueno todos lo conocemos el crianza reserva joven gran reserva autor ecológico fermentado

y en este momento no existe petición al consejo regulador de ampliación de la diferenciación y es rioja alavesa

vinos tiene diferenciados rioja alavesa la que más vinos tiene diferenciados dentro de la denominación de origen rioja y además en ese ámbito de lo comercial el incremento de venta en lineales de supermercados ha crecido un veinte por ciento debido al covid y los hábitos

ha llevado al cliente a adquirir en este canal sus vinos y ahí es donde el gobierno vasco tiene que promocionar los vinos de las pequeñas y medianas bodegas de rioja alavesa ya que las grandes bodegas son las que tienen mayor presencia en ese canal y aprovechan

ese incremento de las campañas o de lo que tiene que ser esa promoción visto las consecuencias

este año es decir en lo relativo al punto cuatro que

internacionalización de estos productos asentando los mercados en los que ya tienen presencia e intentando

está claro que las ayudas para la promoción en terceros países vienen siendo cofinanciadas por la unión europea desde hace años y lo seguirán siendo

es recuperar el mercado interior vasco y español que es donde se ha perdido volumen de ventas debido a que otras denominaciones de origen están entrando con fuerza sobre todo en la línea de vinos de cosechero y de vinos blancos aquí en el mercado interior mercado vasco mercado español

podía haberse recogido y en el último punto en el de favorecer y apoyar a la digitalización de las empresas está bien claro que esto es una

ya se hace conocemos que se hace por parte del gobierno vasco de las diputaciones

que en ese sentido ha quedado reducida y le faltan cosas a esta iniciativa a esta enmienda

como había dicho antes habíamos presentado el reconocimiento por supuesto eso también está ahí la importancia esencial de ese sector de las pequeñas y medianas bodegas de rioja alavesa y habíamos dicho instar

un plan específico de apoyo que permita ayudas directas a fondo perdido eso era importante era importante dejarlo negro sobre blanco y no un análisis etéreo en relación con ya veremos

ese compromiso se podía haber arrancado efectivamente de esa situación y después

de que el gobierno vasco en colaboración con la diputación de álava

regulador de rioja diseñen y pongan en marcha acciones de promoción de los vinos de rioja alavesa

que tenga que ser nosotros entendíamos que es muy importante dar entrada como colaborador

regulador de rioja en este momento y es algo que la enmienda de transacción pues no hace

familiares a las bodegas pequeñas de rioja alavesa y por lo tanto a partir de ahí viene nuestro posicionamiento ante esta moción

no solamente compartimos el interés sino que participamos en las políticas de apoyo asumiendo el mayor de los compromisos posibles para poder ayudar a las bodegas que es comprometiéndonos con la gobernanza y con la aprobación de los presupuestos para que el

no solo sea declarativo sea efectivo sea ejecutivo el sector del vino lo está pasando mal como también ocurre con otros sectores en los últimos años al brexit se le han sumado

después la pandemia y todo ello ha afectado a las exportaciones

por supuesto a la rentabilidad en las ventas o a los problemas

almacenamiento involuntario y por eso quiero hacer una reflexión que se puede titular demasiados problemas tiene rioja alavesa como para sumar más

y me refiero a la pretensión de sustituir su mejor marca de presentación de penetración y de estancia en los mercados en tiendas especializadas en restauración como es la marca rioja son muchas las ocasiones aquí y también

en las que para consumir un vino primero se empieza por vocalizar rioja y después ya aparecen otros detalles

y reconocimiento mundial por una marca totalmente desconocida

no veo qué defensa y apoyo se puede dar a las bodegas de cualquier tamaño que si ya tienen problemas económicos para pagar a precio razonable por la uva

transformar o vender por una mala decisión además tengan que asumir unos costes incalculables

necesite competir con rioja siendo rioja diferenciarse de la bodega colindante siendo del mismo lugar

cuando se comparte suelo clima tipo de uva y método de elaboración señorías generando confusión con el vino de rioja alavesa por alguna que otra ambición particular o por un capricho político no se apoya ni a las pequeñas bodegas ni a las familiares ni a las medianas

así tampoco se apoya el desarrollo rural de la comarca la pervivencia de sus localidades sus servicios públicos o su renta económica

a esta mala idea y es fácil adivinar quiénes resultarán los máximos perdedores

la responsabilidad señorías decía al principio que apoyar a las bodegas pasa más que por hacer declaraciones

y así es como hay ayudas a la promoción del vino y el txakolí para sostener estructura y empleo de las bodegas

en autónomos suspensión de pago a cuenta del impuesto de sociedades dos mil veinte aumento de los gastos deducibles

adaptarse a las demandas del mercado a la comercialización o al ahorro de energía y el apoyo a nuevos canales de comercialización e innovación comercial transformación digital colaboración entre empresas

ayudas procedentes de la unión europea señorías no es lo mismo predicar

apoyar a las pequeñas bodegas a las familiares no se hace atacando a las de otros tamaños se hace con políticas regladas concretas desde el compromiso con eficacia

sobre lo que se trabajaba sobre lo que se trabaja y como se hace desde el gobierno de coalición

transaccional y efectivamente la enmienda transaccional la apoyamos es muy razonable porque insiste en lo que ya se hace y porque suma apoyos a lo que está en marcha como es la mejora de la financiación pública

el impulso al consumo de productos locales y específicamente el vino mejorando y ampliando los escaparates de oferta favorecer su internacionalización

nuevos o el apoyo a la digitalización por lo tanto tenemos una posición

a esta enmienda transaccional como digo está en plena consonancia con lo que se viene haciendo y con lo que queda pendiente por hacer y lo único que espero y deseo es que a los ya

el sector del vino no se le añadan otros por ambiciones particulares o caprichos políticos gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak

desgraciadamente saben lo que es mimar sus cultivos y en el último momento perder la cosecha por culpa de un granizo

viven en una constante incertidumbre fomentada también por los cambios de los mercados con

o los antojos arancelarios de trump a nivel internacional pero también afectados por decisiones ajenas y controladas por un consejo regulador cada vez más unificador si a esa ecuación le sumamos una pandemia que ha causado el cierre de la hostelería las restricciones a la movilidad

atraviesa una difícil situación las bodegas familiares y pequeñas de rioja alavesa centradas en el mercado interior y la hostelería han sido quienes más han sufrido esta incidencia además dependen de sus propias explotaciones pero el campo continúa su ciclo ajeno a la emergencia sanitaria

tienen que seguir afrontando los costes de sus negocios mahastizainak eta upategi txikiak dira egoera horren aurrean ahulenak mahatsa erosten duten

eta horregatik sektorea babestu eta lagundu behar dugu como he dicho el diagnóstico no es bueno y desde nuestro grupo entendemos la necesidad de apoyo a esas bodegas

que están haciendo un gran esfuerzo para apoyar al sector en estos momentos izan ere tapiak zuzentzen duen sailak laguntza sorta bat jarri du martxan beharrak asetzeko

en las que un cuarenta y dos por ciento han ido destinadas a las bodegas de categoría pyme lo que ha permitido una mayor calidad y diseño del producto y de las ventas en el exterior

el sector siempre ha estado respaldado por nuestras instituciones a través de ayudas de distinto tipo y seguirá estándolo y también ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo de hecho ya en junio del pasado año la consejera presentó en la sede de la cuadrilla de rioja alavesa

con acciones de financiación y promoción así el departamento de desarrollo económico cuenta cada vez con más herramientas financieras como los programas lehiatu ardoa sendotu nekafin

pero también ha desplegado iniciativas para impulsar la comercialización del vino de todas las bodegas de euskadi a través de un portal de comercialización

de alojamiento para personal temporero ayudas a la innovación y la digitalización y bajo el marco de ardoa basque wine office herramienta que tiene como objetivo impulsar y promocionar

parte del tejido industrial en las bebidas de euskadi está llevando a cabo iniciativas como el programa promocionar con distintivo basque wine o programa de adhesión gure ostalaritzan

entre otras y desde la diputación foral de álava también apoyan al sector

ayudas a explotaciones vitícolas con una limitación de superficie de cincuenta hectáreas para asegurar

ayudas a la promoción y publicidad de vinos y eventos especiales también

el seguro del viñedo o la agricultura ecológica hasta ayudas para jóvenes agricultores me gustaría recordar también que las ayudas se otorgan en proporcionalidad y según la capacidad inversora es decir quien más invierte más cantidad recibe es lógico y las pymes se financian

hacer creer que se financia más a las grandes frente a las pequeñas es tramposo

también lo mostró recientemente la consejera cuando dijo que no faltarán las ayudas a las bodegas porque tiene claras sus prioridades y el sector vitivinícola es una de ellas a pesar de que hasta ahora el gobierno español su gobierno por cierto señor soto había negado las ayudas a las bodegas el gobierno vasco

unas líneas de ayudas con fondos propios porque usted ha criticado ese reparto que ha hecho el gobierno vasco de las ayudas cuando ustedes ni siquiera las han tenido en cuenta no sé por qué reclaman aquí los deberes que no cumplen allí pero bueno usted sabrá

hemos llegado a una enmienda transaccional que tampoco voy a repetir porque se ha comentado

y bueno el primer punto efectivamente todos reconocemos el valor que tienen

como no podía ser de otra manera y en el segundo punto recogíamos que se analice una línea específica claro obviamente hay que analizarla porque los recursos son limitados y desgraciadamente los sectores afectados por la covid son innumerables por lo tanto bueno primero hay que realizar ese análisis

los puntos tres cuatro y cinco eran muy importantes para nosotros que son los que

enmienda en los que impulsamos al consumo de los productos locales obviamente de nuestros productos y ese proceso de internalización también que es la mayor muestra que podemos

al sector con ese apoyo y por otra parte también favorecer esa digitalización porque está claro que tienen que seguir

consideramos que como he dicho es un acuerdo importante porque seguimos apoyando

tejido productivo y desde el partido nacionalista vasco siempre estaremos

sí que me gustaría decir que evidentemente las instituciones tienen que apoyar a los sectores pero también está en nuestra mano hacerlo y podemos fomentar un mayor consumo de nuestros vinos podemos siempre podemos suena un poco mal pero beber un poco más por apoyar al sector

y creo que deberíamos hacerlo porque les hacemos un favor y además pues obviamente todos seremos mucho más felices besterik gabe eskerrik asko

gracias señora presidenta mucho se va a hablar y se seguirá hablando sobre el mundo del vino y del rioja su denominación de origen

y en definitiva sobre lo que podemos hacer para garantizar un modelo de prosperidad para nuestro campo los políticos

capaz de traer a esta cámara los problemas de la sociedad canalizarlos y si es posible solucionarlos la cuestión al menos así entendemos la vida y los negocios en vox no es pelear por ver quién recibe cuánto sino hacer los negocios viables interesantes para el bolsillo para garantizar el relevo generacional

un poco mejores cierto que no es justo que las grandes corporaciones tengan facilidades

pero se soluciona el asunto con más subvenciones la crisis de la covid diecinueve ha hecho mucho daño a las bodegas de estas características por su modus vivendi

sin embargo no es menos cierto que se trata de un modelo que ya lleva un tiempo en cierta decadencia una decadencia que se manifiesta en el cada vez menor número de este tipo de bodegas con la no sostenibilidad con el abandono de los jóvenes rioja lo tenemos claro sinónimo de calidad de excelencia un vino de rioja alavesa habla de españa y con cada copa de vino de rioja que se toma en el mundo alguien se acuerda de nuestro país y nos da las gracias al viticultor al bodeguero y a nuestra tierra pues aunque apoyamos también el comercio local y la economía de cercanía la sostenibilidad y la prosperidad pasan por mirar al exterior

salgamos a competir hay vino para todos para los de dentro y para los de fuera además como decía la compañera cuanto más

en eso en trabajar por y para la excelencia en garantizar

pero seamos más ambiciosos pensemos en la sostenibilidad

en las generaciones futuras que viven de las fincas tan peculiares que tenemos en rioja alavesa apoyemos la excelencia luchemos por diferenciar el producto claramente

se gasta un sinfín de dinero público en promoción política en exterior pues comiencen a mirar por el producto de nuestra tierra un manjar excelente que garantiza

no usemos el vino como propaganda política y separatista ya que esto es lo que menos necesitan nuestras bodegas eskerrik asko

requiere seriedad primero me gustaría dar las gracias al señor soto por su disponibilidad y por su generosidad

respecto a lo que se puede hacer con el acuerdo pero bueno creo que es un acuerdo importante y vamos a pensar que el desarrollo que se le va a dar va a ser en el sentido de nuestra propuesta al señor barrio reiterarle que a nuestro entender como ya hemos dicho antes la denominación de origen rioja no protege igual a todas las bodegas

y está claro que ellas también piensan que no se les representa

es la respuesta a una necesidad imperiosa dice que la diferenciación funciona bien pero vamos me gustaría saber para quien creo que los datos están bien claros

dice también que la transaccional se ha quedado corta me gustaría saber si hubiera firmado la primera propuesta que le envié que creo que era bastante más explícita

con la reflexión que ha hecho sobre la diferenciación de los vinos de rioja alavesa pero que bueno por supuesto valoro también su disposición y que bueno que está claro que defendemos diferentes modelos y bueno no voy a entrar a discutir a la señora molina decirle

una interpretación igual diferente horregatik beste

para posicionar ese tipo de vino un poquito más especial en canales de venta con esa marca

estamos pagando para posicionar pequeñas bodegas y conseguimos que se posicionen las grandes tirando precios usando dumping con el vino por qué permite el gobierno que esto suceda

sabemos que muchas de las ayudas que se dan al sector vienen desde europa el gobierno vasco no tiene potestad para cambiar porcentajes ni criterios pero eso no pasará con los recursos propios supongo

si se quiere veremos lo que pasa estaremos atentas desde nuestro grupo desde los distintos agentes para ver si efectivamente el acuerdo se lleva a cabo

creemos que la transaccional que hemos acordado es asumible también por el resto de los grupos

una matización la semana pasada se amplió el número de actividades del listado del anexo número uno del real decreto decirle

el gobierno vasco quien ha verbalizado además recientemente que no va a hacer uso del dinero disponible en esas cantidades económicas de las que el gobierno de españa ha puesto encima de la mesa porque consideran que con los recursos propios es suficiente

pone en activo no dos mil quinientos como quería la señora

siete mil por una razón evidente por el impulso de nuestra formación política dentro del gobierno de españa

para fomentar y activar el tejido productivo que suponen las bodegas familiares en la rioja el gobierno vasco ha dicho que no quiere ni un euro que a la vista del acuerdo de hoy que plantea el análisis de la necesidad de ayudas directas terminemos en una conclusión y es que las necesitan y se materialicen

el gobierno vasco va a analizar la necesidad de ayudas directas por tanto esperemos que

y que pasemos a la necesidad evidente de dichas ayudas en cualquier caso bienvenido el acuerdo que aunque desde luego no plantea lo que nosotros en nuestra enmienda

planteábamos como entiendo es el caso de todas las fuerzas políticas que hoy han acordado y han transaccionado en cualquier caso es un mínimo

para poder favorecer al tejido productivo de las bodegas familiares que tan mal lo están pasando y esperemos que en cuanto a la denominación de origen pues tengamos oportunidad en algún momento de debatir de ello como decía el señor

lo habrá pero en cualquier caso creo que hoy no tocaba en relación con los puntos que figuran en la transaccional ni en las enmiendas que en esto

en exceso pero en cualquier caso sí que abiertos desde nuestra formación política a hablar de una cuestión tan relevante como ya se ha hecho en las juntas de álava eskerrik asko

gracias presidenta bien vamos a ver para nosotros

en el debate sobre vinos de rioja alavesa es esencial y como tal pues la vamos a traer a este debate que hablamos de rioja alavesa porque pensamos

la diputación de álava juntamente con los ayuntamientos las empresas con las bodegas es esencial

apartarla o no sé hacerla desaparecer o tener esa intención

rioja alavesa forma parte de la denominación de origen rioja fue fundadora la rioja alavesa de la misma allá por el año

españa alberga las bodegas que ya hemos dicho antes somos en rioja alavesa una comarca pionera en la exportación y referente de los vinos de rioja en el mundo rioja alavesa formamos las hectáreas trece mil quinientos una parte importante por la calidad de nuestros

producimos noventa de los doscientos cincuenta y seis millónes de litros de la denominación de origen todos tienen una calidad extraordinaria y además somos líderes el ámbito rioja en enoturismo o sea que en ese sentido esto es la conexión que hay la verdadera la buena la

hay que hablar con el consejo regulador y hay que ponerse de acuerdo es decir hay cosas

hay elementos pero ahí está la clave de una buena colaboración y de que todo esto en lo que es la internacionalización la promoción vaya adelante en que las instituciones se junten y eso lo echamos de menos lo echamos de menos en los pronunciamientos

del consejo regulador y tal pero cada vez menos o sea que en ese sentido pues nosotros lo echamos de menos

se ha tenido que dar cuenta de algo no porque efectivamente cuando el señor prieto ha explicado la enmienda de transacción qué le ha dicho qué lo ha dicho

pues en relación con la enmienda de transacción insiste en lo que ya se hace

lo que ya se hace es decir que no va más allá no va más allá y eso da qué pensar porque habíamos hablado

decir que estábamos entendiendo que se podía ir un poco más allá concretar

además desde nuestro punto de vista dentro esa enmienda desaparecen colaboradores y actores

bueno pues nosotros pues ahí está se ha hablado de analizar

específico de ayudas o pero ponerlo en marcha porque el análisis

hace un informe en relación con las pérdidas de facturación de los viticultores de las bodegas y ese análisis ya está hecho hay que ponerlo en marcha por eso la

usted se hubiese puesto de acuerdo pues igual hubiesemos votado no pero

lógicamente yo pienso que ha sido un retroceso y

muy de acuerdo como nieto de riojana de elciego yo cumplo con mi parte

y eso se lo digo siguiendo el requerimiento de la señora etxebarria muy seriamente

yo entiendo que ustedes le han metido un gol a bildu en relación con este tema

haber sido un poco más ambiciosos haber dicho que hay dinero

sino vamos a hacer que el parlamento vasco lo ponga en marcha se hable de poner en marcha bueno pues nos hemos quedado en el análisis no veremos a ver nosotros lo seguiremos

la denominación rioja es esencial y ello sabemos que se mantendrá siempre y lo bueno es que todo esto se haga bajo el paraguas de rioja del consejo regulador de la denominación de origen

los debates identitarios entorno a la rioja alavesa son un retroceso y perjudican a las bodegas especialmente a las pequeñas y medianas muchas gracias

decía la señora etxebarria que no quería discutir conmigo en relación con la diferenciación y decía el señor soto que ahora no toca yo les voy a explicar por qué toca ahora y por qué hay que discutir de este asunto qué estamos haciendo en este momento estamos en una cámara

tratando de ver cuáles son los problemas de un sector privado y cuál es la aportación que desde lo público se puede hacer para que esos problemas no generen desempleo problemas económicos

etcétera es decir lo público está tratando de acudir en ayuda de lo privado cómo no va a ser oportuno

políticas que le pueden llevar a lo privado a una parte de lo privado

su número de problemas como es pasar de una marca reconocida mundialmente a una marca desconocida totalmente este es un problema un problema para el futuro de las bodegas que se quieran sumar

es un problema para su economía es un problema para el empleo

un problema para lo público porque a lo público termina llegando y de esto hay que hablar porque de esto la señora etxebarria hablaba en su interpelación que ha motivado esta moción

lo que pasa que lo ha hecho de forma muy prudente bien de acuerdo yo he querido ir un poco más allá por lo tanto es el momento

bodegas con problemas decirles que para que tengan menos problemas lo mejor que pueden hacer es no complicarse la vida sabiendo que el vino de rioja se vende simplemente con decir rioja y a partir de ahí es cuando vienen matizaciones procedencias graduación tipo de uva bueno tipo de uva sí es la misma en fin vienen otro tipo de cosas

de una forma clara y contundente porque como he dicho antes esta diferenciación de viñedos de álava esta caprichosa diferenciación de viñedos de álava es un capricho particular de algunos bodegueros que

y es también parte de un capricho político que lo puede pagar el sector vinícola y también el conjunto de la economía alavesa y vasca y sabiendo aquí que se ha hablado tantas veces

que en lo que realmente somos soberanos en este país es en vino que en lo que realmente somos excedentarios es en vino

acarrearía nos viene como muy bien que seamos capaces de ir a la exportación de vender en euskadi y de vender

y para vender en el resto del mundo hace falta bodegas de tamaño hace falta bodegas que sean capaces de mantener de sostener el suministro del vino allí donde se abren mercados y no de tener producciones muy limitadas

y casi casi casi hasta a escondidas porque no hay suficiente capacidad

no hagamos una guerra entre pequeñas familiares medianas y grandes porque si hay

doscientos familias que tienen bodega vamos a poner por caso

multipliquen por el número que quieran en esas familias y saldrá el número de personas que viven de esas bodegas

bodegas singulares que mueven doscientos trabajadores cien trabajadores y muchos más solo una bodega es decir hagamos una cosa armónica

que rioja alavesa se potencie en su comercio en su población

etcétera es bueno que marqués de riscal sea una referencia en el mundo como lo puede ser guggenheim en la cultura en bilbao oiga es marqués de riscal el que lleva gente y gente y gente no solamente al elciego

también al resto de las localidades por su proximidad y porque un día da para mucho y por lo tanto

y con un poquito de armonía política que parece que tenemos que estar en confrontación entre lo pequeño y lo grande y esto es otra equivocación porque allí donde entra lo grande puede entrar lo pequeño porque las grandes bodegas abren mercados para la exportación

y donde pueden y deben ir acompañados y por lo tanto hay una política que se puede armonizar perfectamente y que sin embargo aquí con una

posiciones políticas se está negando yo apuesto por esto

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor soto el gobierno no contempló esas ayudas al inicio y luego rectificó claro

de que haya rectificado pero es que no les han tenido en cuenta antes y como le he dicho el gobierno vasco se adelanta va por delante y siempre tiene en cuenta a este sector y a otros y por eso tiene partidas pensadas para ellos

que van a venir y lo sabe además es que lo sabe desde luego no va a ser gracias a ustedes pero bueno las habrá etxebarria andrea bueno nos hablaba de seriedad hombre este gobierno créame también que

con el sector tiene igual que el partido al que represento

de la interpretación que es clave claro claro sobre todo cuando se hace mal y de manera torticera porque comentaba usted aquí hablaba del señor luis cañas el señor la bodega luis cañas perdón

de un señor que se llama se llamaba luis cañas y que él solo

vino lo repartía junto a su mujer y ha ido creciendo y evolucionando

un negocio muy muy próspero y muy importante para la comarca y para el mundo y qué pasa que ahora ya no tiene derecho a ayudas precisamente porque sea

habrá que proteger a las pequeñas bodegas pero también habrá que buscar el equilibrio